aprobó la ley cinco barra dos mil dieciséis de modificación de la ley de gestión de emergencias por tanto en cumplimiento de lo que establece la disposición final como consejera de seguridad les presento hoy en nombre del gobierno el texto refundido

la citada disposición establece literalmente que se autoriza al gobierno para que en un plazo no superior a doce meses desde la entrada en vigor de esta ley

y añade la disposición que el texto refundido integrará ambas leyes en un único texto

y disposiciones que fueran necesarias adecuará

y armonizará los textos legales que han de ser refundidos pues bien el gobierno dando cumplimiento a ese mandato dentro del plazo establecido aprobado el pasado día veintiocho de marzo este texto refundido en consejo de gobierno les

de los trámites informes y audiencias preceptivos tanto de la dirección de política lingüística de las administraciones públicas como

asesora el parlamento vasco efectuó una delegación legislativa al gobierno para producir un texto que refundiese armonizase y clarificase el articulado de la ley de gestión de emergencias y esto es lo que hace el decreto legislativo

en primer lugar se integra en un mismo texto los preceptos de la ley

se han reenumerado artículos capítulos y disposiciones se han corregido erratas y actualizado remisiones normativas

se ha procedido a la titulación de los artículos de forma que se pueda identificar fácilmente el contenido material de cada uno de estos artículos y todo ello

en segundo lugar se ha actualizado y revisado el vocabulario utilizando cuestiones o se incluyen en esta actualización cuestiones gramaticales por supuesto para unificar el uso de ciertos términos que se venían usando

y también al objeto de dotarlo de la necesaria cohesión interna por ejemplo pasa esto con denominación del departamento del gobierno vasco competente en materia de

o con las menciones que se hacían al centro de coordinación de emergencias de euskadi o al sistema vasco de atención a emergencias y protección civil igualmente se ha revisado el texto desde una perspectiva no sexista y especial atención merece la versión en euskera en la que sí se han producido mayores cambios

desde la aprobación de la ley original en el noventa y seis hasta la actualidad se han producido importantes avances en el euskera técnico y jurídico y por tanto

en aras insisto a garantizar la seguridad jurídica

está dentro de esos márgenes clarifica y ayuda a los operadores jurídicos para su aplicación y por tanto no quedaba otra que un voto favorable al mismo eskerrik asko

así que si tenemos que resumir la ley en una frase podemos decir que tiene algo de oportunidad perdida

que parece razonable en un primer vistazo pero que no termina de dotar a las emergencias de las herramientas organizativas

para dar una respuesta integral y actualizada a las emergencias el tiempo dirá si tenemos

xedatzen delako indudablemente desde el punto de vista de la técnica jurídica es mejor contar con un solo texto legal en torno a la gestión de emergencia en la ley aprobada en esta cámara hace un año

nos referíamos a la habilitación del texto refundido y autorizábamos al gobierno para que en un plazo no superior a doce meses que lo está cumpliendo desde la entrada en vigor de la ley refundada en un solo texto legal la ley

estamos aquí para ver si en la encomienda que le hizo el parlamento al gobierno lo hizo bien

solo eso que es mucho pero ni más ni menos que eso por otra parte mi grupo euzko abertzaleak quiere destacar que esta iniciativa también supone

gracias señora presidenta egun on guztioi bien la verdad es que este tema pensaran

por parte de esta parlamentaria por parte de este grupo pero nosotros creemos que es más bien al contrario que lo que hay es una cerrazón por parte del gobierno vasco y más concretamente por los responsable de la

creo que en los distintos plenos y comisiones en los que hemos debatido el servicio de emergencias ciento doce todos hemos convenido en que es un servicio esencial

a tenor de lo dispuesto en el artículo diecisiete en nuestro estatuto de autonomía es un servicio de referencia en euskadi como también hemos convenido todos un servicio de calidad y por las propias características del mismo es un servicio

no nos olvidemos que es un servicio de atención al público en momentos de emergencia en momentos duros y que por lo tanto la calidad del mismo debe ser la máxima y como decía la tiene y la tiene fundamentalmente por su plantilla porque

cuenta con unas trabajadoras y trabajadores fundamentalmente trabajadores que son capaces de dar respuesta humana en tiempo récord de forma rápida de forma eficaz que son capaces de empatizar con la persona que está llamando en ese momento y con la situación que está viviendo en ese momento esa persona situaciones en muchas muy angustiosas una plantilla como digo con una gran profesionalidad y que todos también hemos reconocido la consejera en la contestación a mi interpelación vino a decir que el ciento doce era un número de teléfono

su función era y sigue siendo también ahora coordinar

en situaciones de emergencia y además que ello es así se deduce totalmente de la lectura del anterior pliego de condiciones que cuando explica el objeto

estamos pues ante un servicio de coordinación un servicio público y un servicio público esencial porque el carácter público del servicio

nunca es verdad que los servicios públicos pueden satisfacerse de distintas maneras bien sea de forma directa por la propia administración

llevando a cabo una subcontratación como es este caso subcontratación para la que se está preparando el pliego para

por ello en el momento de redacción del pliego es cuando nosotros creemos que es conveniente y necesario recabar todos los datos y de todos aquellos que puedan aportar esos datos que puedan resolver las disfunciones que el servicio presenta en este momento y conseguir ganar en calidad y en eficiencia en ese servicio porque

que tiene una gran calidad pero que también presenta disfunciones y las hemos dicho en muchas ocasiones disfunciones como la plantilla insuficiente en este momento para atender

porque hay llamadas que se pierden hay llamadas que no pueden ser atendidas por falta de personal suficiente además el tiempo de respuesta en ocasiones no es el adecuado con lo que ello supone como he dicho en otras ocasiones y quiero reiterar ahora cuando uno llama al

es vital y además cada segundo que pasa también puede ser vital para la respuesta que se da ante esa situación de urgencia el número de llamadas ha ido aumentando

disminuir con lo cual la calidad del servicio se ha visto resentida

las sustituciones como he dicho en otras ocasiones se cubren por las propias trabajadoras con la pérdida de sus propias horas de trabajo y de descanso debe por tanto garantizarse la existencia de ese servicio

pliegos en esos pliegos debe fijarse cuál es la estructura de personal necesaria para la prestación adecuada del servicio y en caso de que sea necesaria su ampliación

también se debe de garantizar planes de formación y de reciclaje del personal así como la subrogación de las trabajadoras porque además de que

porque como he dicho en muchas ocasiones no es un simple número de teléfono es necesario tener una serie de conocimientos una serie de preparación exigidos en el propio pliego de condiciones y que realmente esos conocimientos y esa preparación quienes mejor la tienen en este momento

que por lo tanto interesa que continúen en el mismo pero que continúen con el mantenimiento de todos sus derechos y sin perder su antigüedad y nuestra legislación

como también hace posible la inclusión de cláusulas sociales en beneficio de las personas que presten el servicio y por lo tanto también en beneficio de la calidad

señalaba la señora consejera cuando me contestó a la interpelación que estaría de acuerdo con ella

no es que no esté de acuerdo es que estoy radicalmente en desacuerdo con ella en ese punto nosotros consideramos conveniente la reunión creemos que recibir a las trabajadoras no supone una interferencia en absoluto

de la mano de quien está al frente del servicio todos los días por parte del departamento y por parte de sus

tiene dicho servicio supone un conocimiento de las carencias y de las necesidades que llevaría a la redacción de un pliego de condiciones más adecuado

de un servicio en mejores condiciones para las personas que prestan el mismo y que por lo tanto como digo redundara en beneficio de dicho servicio se lo dije a la señora consejera y ya que está aquí aprovechando lo quiero reiterar un gobierno que se jacta de la atención a las personas no entendemos que se pueda cerrar en banda a recibir a un colectivo de personas pero además a un colectivo de personas

tan esencial como se ha puesto aquí de manifiesto en otras ocasiones si esa reunión se hubiera dado

hace meses probablemente ese tema este tema nunca se hubiera debatido aquí probablemente no se hubiera traído aquí a debate el tema se trajo a debate precisamente porque las trabajadoras

y no ha habido manera se aludió en un primer momento a problemas de agenda a que no se les daba cita a esas trabajadoras porque la agenda estaba

a nosotros nos parecía que por muy apretada que este la agenda de un consejero o de un viceconsejero yo creo que sacar un tiempito para reunirse con una representación de las trabajadoras

se dijo claramente que no que no era una cuestión de agenda que no era una cuestión de tiempo sino lo que había es una negativa

porque es verdad que en un primer momento parecía que el viceconsejero cuando en su apretada agenda encontrase un hueco se iba a reunir con la representación de las trabajadoras la cerrazón es total y no está dispuesta a recibirlas en ningún momento y nosotros insistimos para todas las carencias que tiene el servicio o para intentar

creo que la reunión de las trabajadoras no es que no interfiera sino todo lo contrario que conocer sus demandas conocer sus problemas obtener información

recibir a unas trabajadoras no quiere decir darles la razón en todo no quiere decir asumir de manera íntegra sus peticiones

porque son las que están prestando de primera mano el servicio y nadie mejor que ellas conoce el mismo finalmente hemos firmado una enmienda con el grupo elkarrekin podemos en el que además de solicitar que se reconsidere esa cerrazón

una reunión volvemos a plantear cuestiones que ya salieron aquí en otros debates que creemos que son importantes que creemos que es

y que deben quedar garantizadas para que de esta manera

no me extiendo más creo que el tema es claro creo que el tema es justo y espero

bai mila esker lehendakari andrea egun on denoi la verdad es que no me voy a alargar yo tampoco en este asunto porque

para poner solución a este conflicto laboral de las trabajadoras del servicio de atención de emergencia y ya en aquel momento se detalló

pero nada ha cambiado desde entonces para este colectivo hoy pedimos que hasta tener resuelto un nuevo contrato se medie en el conflicto de estas trabajadoras con la empresa además de recordar que en nuestra enmienda de transacción ahora transada con el partido popular

también y dado que se han aprobado los presupuestos y dicha partida se ha visto incrementada que dicho incremento se destine íntegramente

recordamos que la plantilla de este servicio percibe unos salarios medios de mil euros no se contempla ningún tipo de plus por traslados a pesar de vivir en distinto territorio territorio donde se ha centralizado dicho servicio una plantilla que perdió todos sus derechos de antigüedad adquiridos durante veinte años al no incorporarse en el anterior pliego la subrogación como si fuese cosa nimia la subrogación una plantilla adherida al convenio de telemarketing equiparando a un vendedor de productos

en definitiva una plantilla sometida a la precariedad laboral y por lo que llevan meses luchando para resolver esta situación hasta que agotadas todas las posibilidades de negociación

dejándoles sin capacidad por ello de poder ejercer ningún tipo de presión

muchas obligaciones y pocos derechos para estas trabajadoras y trabajadores no me gustaría tener que pensar que tenemos un gobierno que mira hacia otro lado cuando hablamos de pérdida de derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras de precariedad laboral de pérdida de la calidad del servicio de emergencias

base de soporte tecnológico y logístico para comunicar y facilitar la coordinación de los distintos servicios que tengan que intervenir en emergencias de todo tipo conforme a lo que dispongan

y las tácticas operativas correspondientes y por ende le corresponde prestar el servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número telefónico único

y es precisamente esta calidad del servicio la que no puede apoyarse únicamente en los hombros de los y las trabajadoras debe ser la administración quien asegure dicha calidad y por ello es necesario mejorar la calidad de la contratación pero de verdad que no se quede en meros titulares

son mujeres llevan demasiado tiempo luchando al mismo tiempo que sustentan un servicio tan importante y sin que hasta la fecha este gobierno haya hecho por mediar en este conflicto creemos que nunca es tarde si la dicha es buena aunque hubiese estado bien que la consejera de seguridad

lo hubiese hecho hace tiempo incluso pudiendo evitar una huelga solo hacía falta voluntad política

es decir no hay incumplimiento legal que impida dicha mediación es solo cuestión de voluntad política señora consejera nada más mila esker

cerraba la intervención el portavoz de eh bildu diciendo que van a votar a favor

porque esto ya viene de hace tres meses yo creo que

dos semanas desde esta tribuna nos acusaban a los socialistas de que nos plegábamos a los demonios del partido popular

presupuestarias del partido popular a la par que sin complejos

de que contaminábamos no sabíamos muy bien el qué con ese acuerdo al que llegábamos

porque llegan a mínimos eso sí porque llegan a mínimos y porque pretenden pasarnos no sé muy bien por qué lado a partidos como el mío

y que no es otra de que se incorporen como cláusulas sociales el respeto escrupuloso a los derechos laborales que tienen los trabajadores y que se les reconoce por la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y las patronales de los sectores en las empresas subcontratadas y que espero que lo que pacten

no responda a la reforma impuesta unilateralmente por el gobierno del partido popular

sino que esto lo hagan en base al espíritu de mejora pactada de las condiciones laborales de los trabajadores que era la forma

alguien decidió con mayoría absoluta en otro parlamento

ese instrumento a las centrales sindicales y por tanto lo que hacemos ahora es entrar a dar cobertura aquí a quien se define con un entusiasmo proletario

yo espero que ese entusiasmo proletario a algunos les dure hasta dentro de tres escasos días y el día uno de mayo pueda saludar a alguien conocido desde hace cierto tiempo en la manifestación del día de los trabajadores

alguna chica allí por primera vez en su vida ya que esta tribuna la utiliza

de los trabajadores y voy a entrar ya en materia porque como se ha dicho hace escasamente tres meses

según nos decía su proponente para que se conocieran las reivindicaciones de las trabajadoras de este servicio y esas reivindicaciones se desgranaron en las distintas intervenciones que se hicieron y fueron escuchadas

que lo tienen de aquel debate sí es cierto se aprobó una proposición no de ley que no incorporaba nada con respecto a una reunión de la responsable del área de seguridad fundamentalmente porque poco sentido tenía instar a una reunión cuando llevábamos una hora y media en este parlamento hablando de las reivindicaciones y del servicio

incorporaba algunos puntos que los propios proponentes conocían de antemano que resultaban de imposible cumplimiento según el ordenamiento jurídico vigente pero eso daba igual daba igual porque la cuestión que se quería dejar patente era otra y para eso poco importaba que lo que se aprobara fuera viable o no en el último pleno de control el partido popular quijote del ebro para arriba en la defensa y atención a los derechos de los trabajadores habría que ver lo que hacen del ebro hacia abajo

que a pesar de la apariencia yo creo sinceramente que no responde a un interés en la gestión concreta del servicio de atención de llamadas de emergencia

el pasado mes de enero y lo digo porque he leído y releído de una forma minuciosa las intervenciones que se produjeron en la sustanciación de aquella interpelación y no veo

yo por este motivo he presentado junto con el grupo nacionalista una enmienda para intentar reconducir esta moción a algo posible a algo legal a algo oportuno y sobre todo útil para los intereses de las trabajadoras que prestan este servicio de atención de llamadas de emergencia porque tenemos la convicción de que los pliegos de condiciones deben recoger cláusulas sociales las legales y necesarias para que se garantice la subrogación de la plantilla en la que coincidimos el dimensionamiento adecuado de la misma para una óptima prestación de la misma

y la formación continua del personal no estamos tan separados pero a pesar de no estar tan separados y a pesar de haber presentado una enmienda en ese sentido no hemos recibido

una propuesta transaccional con nosotros por qué no sé alguien me lo explicará y queremos que todo esto se realice en el menor tiempo posible para que con la nueva adjudicación se garantice desde la administración el respeto de los derechos laborales que por convenio colectivo por convenio colectivo

de llamadas yo también podría alargar algo más mi intervención y repetir argumentos dados en la intervención que tuve hace tres meses que siguen plenamente vigentes o desgranarles cómo se comportan algunos de los grupos cuando gobiernan y no están en la oposición y del ciento doce se trata

o también podría explicarles por qué hoy se encuentra debilitada hasta límites insospechados la negociación colectiva pero no creo que merezca la pena porque

o revisar las actas de la comisión de trabajo y justicia donde nos han clarificado meridianamente qué es la negociación colectiva quiénes son sus protagonistas en qué circunstancias se encuentra y quién le dio la puñalada mortal a la garantía de los derechos de los trabajadores

y el culpable de todo esto está en la reforma laboral aprobada por el partido popular en mayoría absoluta en el dos mil doce ese con el que aquí no les cuesta a ustedes nada transaccionar una propuesta de defensa de los derechos de los trabajadores que ellos han cercenado en fin

pero tengan claro tengan claro que el terreno de juego y las reglas las han marcado ellos en madrid y salvo que ustedes quieran allí cambiarlas aquí
solamente bailarán al son que ellos están marcando muchas gracias eskerrik asko castelo andrea

que en su iniciativa parlamentaria de fórmula interpelación recibió de la consejera de seguridad la señora llanos nos trae hoy aquí una moción tan carente de sustancia como necesitada de argumentos y no lo digo porque sea usted poco partidario de la acción de este gobierno

las criticas cómo no son aceptables sobre todo cuando se hacen con la intencionalidad de mejora pero cuando se critica por criticar

pierde toda credibilidad sobre todo cuando no hay detrás ninguna propuesta constructiva seria señora llanos usted no puede con su gusto craso y su garbosa mendacidad eludir la vacuidad de su iniciativa porque he de decirle señora llano que he buceado en los plenos de estas dos últimas legislaturas

con moción alguna de tan escasa entidad nos vemos otra vez en este debate cuyo objeto nominal es pedir a la consejera una reunión con las trabajadoras del servicio de atención de emergencia sos deiakminus ehun eta hamabi supuestamente para que la consejera conozca de primera mano

marcha y la óptima eficacia del servicio algo que la consejera ya conoce por otra parte porque no en vano el colectivo que dice defender se ha reunido con todos los grupos parlamentarios se ha reunido con responsables del departamento de seguridad el colectivo ha convocado una huelga

y difundido ampliamente sus reivindicaciones y porque este debate se sustanció en esta cámara hace exactamente

y usted de manera tramposa retorciendo el reglamento vuelve a suscitar el debate

un enunciado diferente pero que reitera sofismas y argumentos de medio pelo

no pretende lo que dice sino que pretende el desgaste de la figura de la consejera ni más ni menos pero eso parece importar bien poco a quienes están habituadas a nadar en la procerosas aguas de la mendacidad aun en estos tiempos de deshielo

las trabajadoras de sos deiak no quieren expresar a la consejera

sino exponerle su tabla reivindicativa y exigir una mejora de sus condiciones laborales cosa legítima por supuesto pero no es la consejera

el decreto de estructura que usted debe conocer y si lo ha leído

tiene unos cauces establecidos con recursos técnicos y humanos puestos a esa disposición para que la buena marcha y control

sin ánimo de caer en su trampa y reproducir el debate habido aquí en enero

ya que insta al gobierno vasco a finalizar a la mayor brevedad posible la tramitación del expediente correspondiente para la contratación del servicio de atención telefónica de emergencias

contemplando las cláusulas sociales que garanticen unas condiciones laborales dignas a los trabajadores y trabajadoras entre otras la subrogación de la plantilla la formación continua y las coberturas de bajas o ausencias

mucho más concreto mucho más realista en todo caso usted que suele alardear de la coherencia del partido popular

test de agudeza auditiva vamos a ver si es capaz de adivinar quién dijo exactamente esto apoyamos sus movilizaciones

esenciales para la ciudadanía que no se están prestando en condiciones dignas también se critica el silencio absoluto y falta de diálogo del gobierno para con los trabajadores

se niega a recibir antes del traslado a la nueva sede de emergencias

haciendo referencia podría ser al gobierno vasco pues no está haciendo referencia a la xunta de galicia

la vicepresidenta de la mesa del parlamento gallego y diputada de en marea confluencia de podemos eva solla

llanos y también al grupo de elkarrekin podemos por supuesto que esto ocurre nada más y nada menos que en galicia que pasa por ser la reserva espiritual del partido popular con un servicio subcontratado

y en fechas tan recientes como el diez de abril

escasamente dos semanas y se lo dice la portavoz parlamentaria

confluencia de podemos en respuesta a algunas de las manifestaciones

el portavoz de elkarrekin podemos señor bollain calificó al partido popular de antisocial

de ser los líderes en recortes de favorecer a las elites económicas y de propina nada más y nada menos que ser el partido más corrupto de europa

y que les gusto el calificativo que les di el pasado

ahora creo que es más apropiado el título de esa comedia de enredo tan española por otra parte los extremeños se tocan les pido coherencia

en el fondo y en las formas y en las formas porque no es de recibo que los que piden un cordón sanitario no es de recibo señores de podemos que los que piden un cordón sanitario alrededor del partido popular en esta ocasión

merece la pena traer este tema aquí aunque solo sea por su utilización del diccionario español y la profusión de adjetivos que me ha dedicado vamos creo que le han faltado pocos

ustedes con el partido popular yo no sé esa no sé

satanización de los acuerdos a los que podemos llegar con elkarrekin podemos les parece oiga nosotros en esta cámara podemos llegar a acuerdos podemos hemos llegado con ustedes llegamos con el partido socialista podemos llegar a acuerdos coincidir en votaciones

ya entiendo que a ustedes les gustaría aislarnos pero es que

no les va a salir la jugada yo a la señora castelo le tengo que decir que si toda la culpa toda la culpa del mal funcionamiento del servicio ciento doce la tiene el gobierno del partido popular

que la señora consejera se hubiera reunido con las trabajadoras para decirles la culpa de esto la tiene toda el partido popular porque vamos y el gobierno de españa porque vamos cosa que más les guste no hay no hay que poder echar las culpas a otro y ya si es el gobierno de españa y el gobierno del partido popular vamos miel sobre hojuelas con lo cual no hubiera tenido ninguna pega

es lo que nosotros pedíamos aquí pues yo no sé si la propuesta será tendrá una gran vacuidad o no la verdad es que no me importa en absoluto los términos en los que usted se ha referido como propuesta vacua simplista sí no me interesa en absoluto

ni a que usted me venga y diciendo que propuesta más elaborada o que parlamentaria

yo vengo aquí a plantear una cuestión que creo que es posible que creo que puede beneficiar primero a los trabajadores vascos que están en el ciento doce y luego pueden redundar en beneficio de todos los vascos

porque la reunión que la consejera puede hacer con las trabajadoras pues puede ser además de

sus condiciones laborales que por qué no porque como le digo resolver esas condiciones laborales conseguir las condiciones laborales óptimas redunda en beneficio del servicio

es que yo no entiendo esa cerrazón si yo no tengo que desgastar a la consejera si la consejera se desgasta sola se desgasta sola porque vamos

es palmaria y notoria con lo cual yo no tengo aquí que venir a decirle nada

yo aquí claro que no introduje más que la petición de la solicitud de esa reunión porque sobre le otro asunto ya había habido un acuerdo ahora

y algunas de las cuestiones están recogidas en esa enmienda de transacción

yo no soy extremeña yo tengo sangre andaluza y sangre alavesa con lo cual yo en mí misma soy una extremeña que me toco o

de verdad y yo señora castelo dice usted que a ver si me ve detrás de una pancarta mire yo ya comprendo que ustedes es que en eso son expertos cuando salen en el gobierno dicen una cosa

y cuando estaban en la oposición una bien distinta y bueno al señor latxaga le puedo decir porque si yo le saco aquí

parecerían que eran mías o de elkarrekin podemos

por la reunificación del ciento doce y el mal funcionamiento del servicio

usted pensaría que las había dicho yo o elkarrekin podemos en el pleno pasado y lo que le decía señora castelo ustedes también son expertos en no hacer absolutamente nada en el gobierno

en cuanto pasan a la oposición en cero coma dos

es que los derechos por supuesto que se pueden defender en una manifestación pero los derechos también se defienden en este parlamento y eso es lo que ha hecho este grupo

yo creo que hay algo claro y que si se trae el tema de nuevo a esta cámara es porque

y creo que añadimos algo que es la mediación de la consejera en lo que creo que hablando no perderían nada me deja perpleja tanto escepticismo para

qué hay de malo que hasta redactar el pliego la consejera se reúna con este colectivo que incluso podría ayudar a mejorar la redacción de dicho pliego

perfectamente cómo se tiene que ofertar dicho servicio repito que el señor urtaran ya lo hizo con otro conflicto y no hubo ningún problema ante ello por cierto señora castelo yo tampoco he recibido ninguna llamada suya para poder transar

y señor latxaga de cordones sanitarios yo no voy a hablar no voy a desvirtuar las demandas de un colectivo de trabajadoras

sentido será aquí y en cualquier sitio para las trabajadoras de aquí y de cualquier otro lugar
veremos que hacen ustedes en los presupuestos del estado mila esker eskerrik asko macazaga andrea eh bildu otero jauna zurea da hitza

berriro esateko señora castelo no ha cumplido su palabra ha dicho que no va a ser irónica pero al final es que no le queda otra no le queda otra me recuerda usted a la fábula de la rana y el escorpión

que queda claro la verdad es que es difícil de entender

es fácil de entender pero lo que es es difícil de interpretar su posición es fácil jugar aquí al y tú más con el partido popular cuando la famosa y nefasta reforma laboral del partido popular que usted alude fue simplemente

con la reforma anterior y la situación que hoy estamos padeciendo con el servicio de ciento doce viene derivada en muy buena medida

de aquellos pliegos que salieron cuando

en el gobierno y que en su día aquella restructuración

criticó el partido nacionalista vasco pero después es curioso como aquí unos se van pasando la pelota a los otros de por qué hemos llegado a esta situación

la situación que tenemos que es realmente lamentable y es verdad que aludir

intentando hacer mofa no creo que en este caso en este caso porque estamos hablando de un caso concreto en un lugar concreto

irristatzen hasten gara porque aquí habláis de

dignas pero claro lo que no nos estáis diciendo es qué pensáis sobre las condiciones laborales actuales porque las condiciones laborales actuales son indignas eso es lo que pensáis para que lleguen a unas condiciones laborales dignas o por el contrario

son ahora dignas con lo cual lo que cobran no tendría por qué cambiar yo creo que es muy importante que aclaréis este punto cuando habléis de condiciones laborales dignas

laborales dignas y con esto termino y cuando yo decía en mi primera intervención

me refería a y voy a sacar el papel

y hablo del miércoles dos de diciembre del dos mil quince boletín oficial del país vasco

para registro publicación y depósito de convenio colectivo para la empresa ute gsr televida para los años dos mil quince dos mil dieciséis y dos mil diecisiete aquí

de la cantidad de dinero que van a recibir y después habla de las categorías y aquí habla de la categoría de teleoperadores en este convenio es un convenio propio

es decir perfectamente equiparable el tipo de trabajo que está inserto

recogido en el anexo de las tablas salariales para el dos mil quince con sus correspondientes aumentos del tres por ciento para el año dos mil dieciséis y dos mil diecisiete

esto se puede proponer y esto se puede empujar y esto es al fin y al cabo lo único que está pidiendo el colectivo de trabajadores y trabajadoras del

y es lo que parece que no os conviene empujar besterik gabe

pues estamos en lo mismo de hace tres meses una reunión previa cree que es conveniente la señora llanos para conocer de primera mano cómo funciona dicho servicio mentira

de las trabajadoras vale es decir eso es lo que hay porque cómo funciona el servicio se conoce ya se lo han explicado porque existen controles previos auditorías internas y externas y porque ellas en su plataforma de reivindicación y en la reunión con los distintos grupos políticos

no sea adecuado y que no lo estén prestando correctamente fundamentalmente porque lo hacen bien y lo hacen de una forma profesional lo que están reivindicando son mejoras laborales salariales pluses se lo dije y ustedes lo tienen por escrito y no solamente ustedes

empresa que tiene la adjudicación actual y lo conoce también la consejería

para no reunirse y tal yo le recomiendo algo le han indicado pero yo le voy a recomendar que lea usted meta en google el faro de vigo y la voz de galicia

y ven ustedes cómo se comporta el partido popular donde no están en oposición que a mí me da igual con quien hagan ustedes acuerdos porque para eso estamos en un parlamento lo que me parece es un poco incoherente proponer aquí lo que se niega allí y me parece indecente que cuando ustedes cercenan la negociación colectiva y le quitan el instrumento fundamental a los sindicatos y pierden los trabajadoras la ultraactividad de los convenios y lo ha tenido usted que escuchar como lo he escuchado yo en la comisión de trabajo y justicia me venga aquí proponiendo

allí en madrid entonces a mí la coherencia y la decencia me parecen importantes

cuando se dice por parte de podemos que no ha cambiado nada no es cierto porque los pliegos de condiciones están redactados y en tramitación administrativa es decir se están sometiendo en este momento a los controles de legalidad oportunos por tanto eso que usted me decía de me parece correcta la reunión hasta que se redacten los pliegos de condiciones bien

ya están cerrados y están en tramitación administrativa por eso lo que pedimos en nuestra moción y se lo hubiera podido explicar si hubiese tenido a bien ya no solamente que yo la llamara porque normalmente quien llama

es el grupo que ha tomado la primera iniciativa el grupo proponente inicial y a partir de ahí no sé si usted llamó al partido popular para llegar a un acuerdo con ellos o el partido popular fue el que se dirigió a usted

han intentado ni antes ni ahora llegar a un acuerdo con nosotros el por qué

explicar cuando me hablan de que quieren que se medie ustedes quieren mediar o lo que quieren es que el gobierno vasco negocie un convenio porque eso no le corresponde y eso lo saben perfectamente todos una cosa es mediar e impulsar y eso sabes a quién le corresponde pues a los sindicatos

y me quieres decir o queréis que yo conteste si cuando un sindicato

aprueba un convenio firma un convenio las condiciones que está acordando en ese convenio son indignas

porque yo creo que no yo creo que no lo que digo es que son muy legítimas las reivindicaciones de los trabajadores para mejorar las condiciones a través de la negociación colectiva porque así ha sido siempre y a pesar de que nos hablen de la necesidad de una nueva actualización de la forma de negociar tiene que ser a través de esa negociación como se vayan mejorando las condiciones laborales de los trabajadores que no solo tienen por qué ser mejoras económicas porque pueden ser también de otro tipo por eso bueno en el tema de qué es digno y qué no es digno sería algo que no me correspondería tampoco a mí centrarlo en este momento y por último la coherencia

que la conozco pero yo le recordé a usted en aquel momento y hoy tampoco lo ha querido hacer cuál fue el comportamiento que eh bildu tuvo con el servicio de atención

cuando aquí me dice que lo que ustedes van es por la publificación de este servicio y que se preste de forma directa

oye el papel aquí lo tenemos todos se lo dije en su momento y se lo repito hoy porque parece que de aquello no se ha enterado y luego es muy fácil venir aquí a pedir y consensuar con otras fuerzas políticas pero cuando el ayuntamiento de barcelona hace poquito ha tenido también que readjudicar el diez de atención telefónica

dijo que le parecía y compartía las reivindicaciones de los trabajadores pero que la ley le impedía

por tanto coherencia pues para todos nosotros en este caso no apoyaremos lógicamente la moción presentada y votaremos en contra de la misma

le pido calma le pido calma y tranquilidad ya sé que son tiempos difíciles para el partido popular y que tiene que sacar fuerzas de flaqueza

se tocan no era nada en contra de los extremeños es un juego de palabras de esa comedia de enredo y tiene que ver con los extremos que se tocan en este caso el partido popular y sus amigos sus colegas de elkarrekin podemos

por su parte y por parte de otros se hace referencia a lo que se aprobó en enero bueno en cuanto a la réplica en este punto tengo

se ha encargado él solo de decir que algunos de los puntos eran incompatibles entre sí con lo cual

pero yo he de decir otra vez que aquel acuerdo esa enmienda de transacción era un monumento a la incoherencia porque instaba

viabilidad económica de incorporar el servicio vasco de emergencias a la estructura de la administración general y luego pretendía incluir

una y otra difícilmente se pueden casar esa es la cuestión que le tenía que comentar

eh bildu también se ha hecho algunas referencias aquí con esas incoherencias parece que la señora llanos

y todos los que tienen querencia por la pancarta que decía la señora llanos

pues lo que tienen la querencia por la pancarta la sigan con tal de lograr sus fines y era precisamente

hace un par de semanas casanova jaunak zera esan zuen orain dela hiru aste

dagokion tokian dago eta toki horretan jarraitu beharko luke por si quedaba alguna duda a alguien de esta cámara lo repitió en castellano

está cada vez más marginado política e institucionalmente en este país y así debe seguir dijo usted señor casanova

es más su portavoz parlamentaria señora iriarte ha dicho esta misma semana que su grupo cursará

en el parlamento vasco para tratar los perjuicios causados por las políticas del pp en euskal herria

unos escraches anticorrupción en frente de las sedes del partido popular yo lo único que pido en este caso es coherencia

lo que no se puede pedir a unos es que se haga un cordón sanitario en torno al partido popular

en el caso de elkarrekin podemos firmando una transaccional o en su caso votando a favor porque como decía el señor otero pues coinciden en el voto pero la coincidencia no es casual no hay causalidad

esta coincidencia esta buscada y bien buscada por la señora llanos y por los representantes del partido elkarrekin podemos hay casualidad en estas coincidencias y

que no se haga absolutamente nada con el partido popular y a otros demonizándolos en algunos casos demonizándolos y en otros casos

pasado absolutamente nada firmar acuerdos les pido coherencia a eh bildu le pido coherencia a elkarrekin podemos

a la señora llanos y al partido popular porque ustedes por cierto no me ha dicho nada de lo que ha pasado en galicia con una mayoría absoluta del partido popular

pero a ver estamos hablando de un conflicto de similares características con el mismo servicio

en el mismo espacio temporal o sea hace un par de semanas

mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

egun on gracias señora presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías bien esta moción está planteada en coherencia con lo tratado en la interpelación formulada

consejera de este gobierno y presidenta del consejo rector de la sede española de la fuente europea de neutrones por espalación

y hemos presentado la moción correspondiente

interpelación nuestro propósito es el traslado de lo tratado

de la interpelación de aquella preocupación manifestada en relación con la actitud del gobierno vasco y su compromiso con el desarrollo de la fuente europea y su sede en bilbao en el que gobierno vasco se comprometa

en serio con el desarrollo con las exigencias definitivas presupuestarias operativas y de concepto en la construcción y puesta en marcha de la infraestructura mencionada y se haga a la vez al unísono de acuerdo

la secretaría de estado de investigación desarrollo e innovación ya ha manifestado su voluntad de hacer ese recorrido ahora falta que el gobierno vasco

confirme su confianza en el proyecto científico europeo y actúe en consecuencia algo que no nos quedó muy claro en la sustanciación

el consejo rector de ess bilbao en su reunión de doce de junio de dos mil quince aprobó entre otros un acuerdo para la participación española y un borrador de adenda al convenio de colaboración de dos mil diez

en el acuerdo se pactó que una vez se formalizara oficialmente la participación española las administraciones consorciadas llevarían a cabo los respectivos trámites internos

el acuerdo del consejo rector para la modificación del convenio de creación del consorcio

que el importe mínimo de desembolsos que deberá hacer cada una de las administraciones entre dos mil diecisiete

veinticinco para gastos de construcción será de cuarenta y cuatro coma veintidós millónes de euros adoptar esos acuerdos la secretaría de estado de presupuestos y gastos

sobre esa adhesión en el informe se afirma que el acuerdo internacional a través del que se formalizaría la participación de españa en ess eric requiere la financiación presupuestaria adecuada y suficiente lo que en principio se garantizaría con la previa suscripción de la citada adenda la secretaría de estado

la secretaría de estado de investigación desarrollo e innovación ha reiterado en múltiples ocasiones el intento de entablar negociaciones para consensuar y aprobar una adenda de modificación del convenio que plasme los acuerdos a los que las administraciones llegaron

y que permita cumplir con los requisitos previos necesarios para la integración en

no ha accedido hasta ahora a modificar el convenio los argumentos utilizados por los representantes del gobierno vasco culminan en todas sus comunicaciones de respuesta a la secretaría de estado en que están a la espera de que la administración general del estado tramite suscriba

que se ha adoptado en el consejo rector de ess bilbao de doce de junio dos mil quince

en las condiciones pactadas la aprobación de la adenda al convenio de colaboración

es el paso previo imprescindible para que españa solicite su adhesión como socio fundador en el ess eric la adenda debe contener el cuadro de financiación dos mil dieciocho dos mil diecisiete bi mila hogeita bost el consejo de eric aprobó una nueva prórroga

pero imponiendo como condición que no se incumplan ninguno de los plazos de entrega de los paquetes de trabajo que tienen asignados ess bilbao

la firma de la adenda cuyo texto está elaborado y es conocido por el gobierno vasco

para poder hacer frente a los compromisos adquiridos en dos mil diecisiete además la administración general del estado ha incluido en la propuesta de presupuestos generales del estado del dos mil diecisiete una propuesta normativa que autoriza el endeudamiento de ess bilbao en dieciocho millónes de euros que sería cubierta con cuatro millónes de fondo feder y con catorce millónes de euros a cargo del capítulo octavo del presupuesto de los gastos de la secretaría de estado de investigación

de las dos administraciones en dos mil dieciocho dos mil veinticinco al cincuenta por ciento la tramitación de prestamos de esa cantidad una vez aprobados los presupuestos generales del estado dos mil diecisiete requerirá la aprobación previa del consejo rector

que dispone de uno de los dos votos de ese órgano rector es decir aquí estamos hablando de la capacidad y lo que tiene que hacer el gobierno vasco estamos en el parlamento vasco señor becerra y tiene que ser el gobierno vasco también el que tiene que actuar prioritariamente el gobierno de españa ya está haciendo

es decir acuerdos y compromisos que hay que desarrollar por parte del gobierno vasco no sé si por parte de la señora uriarte por parte de la señora tapia pero por el gobierno vasco que tiene esa asignatura pendiente y usted señora

y de que van a cumplir lo pactado por ello

la moción consecuencia de interpelación hemos presentado una moción hemos visto que hay un texto de transacción pero nuestra moción era clara nuestra moción instamos al parlamento vasco instábamos gobierno vasco y decíamos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco

la que nos preocupaba en la interpelación señor becerra era la actitud del gobierno vasco fundamentalmente la que nos preocupaba en aquel momento el parlamento vasco insta al gobierno vasco

acuerde con el gobierno de españa la tramitación de la solicitud de ingreso

porque eso iba a ser así la adenda la normal tramitación

se había concebido toda esta actuación desde el principio desde que la señora celaa era consejera y además estaba

en este proyecto y cómo se ha ido desarrollando desde entonces y asimismo se instaba al gobierno de españa también y al gobierno vasco en relación con esa cuestión

formaba parte de la adenda los compromisos y calendarios de financiación tanto las necesidades

construcción equipamiento de la sede española de la fuente europea de neutrones por espalación concretando las respectivas aportaciones del periodo dos mil dieciocho dos mil una moción muy clara muy concreta en relación con la preocupación que nosotros habíamos mantenido y habíamos manifestado en esa interpelación por la actitud del gobierno vasco esa actitud de desconfianza esa actitud de paso atrás

identificado y en ese sentido presentamos esa moción esa moción que vamos a mantener independientemente de lo que podamos hacer también con la votación de la enmienda de transacción que se nos presenta la enmienda de transacción

primero al gobierno de españa no buscando un concierto no buscando el acuerdo ya haciendo una instancia directa al gobierno de españa diálogo al que el gobierno de españa ya se ha comprometido si el gobierno vasco le da las garantías

si se acuerda lo que queda pendiente pero bueno vamos a entender que podemos suscribir la cuestión

de españa como socio fundador del consorcio europeo de infraestructuras podemos entender que es así bien me gustaría que hubiese habido en esa redacción un poco más de acuerdo un poco más de sensibilidad pero bueno parece que no ha sido posible supongo que

influido lo suyo y yo tenderé además tenderé una vez vea el gobierno de españa esta iniciativa lo primero que haga decir

del parlamento vasco para decirnos que hagamos esto gobierno vasco gobierno de españa vamos a hacer esto estamos de acuerdo vamos a negociar porque

con vosotros y eso tenía que haber sido más claro señor becerra en la definitiva enmienda de transacción

a favor de la enmienda de transacción pero no es justa esa enmienda de transacción señor becerra no es justa esa enmienda de transacción se le da la carga al gobierno de españa

le aseguro que a renglón seguido no sabemos lo que puede pasar por mucho que el parlamento vasco tenía que haber sido más decidida esa moción desde luego nosotros votaremos a favor de la nuestra entenderemos que hay que facilitar también el hecho de que sigamos dando pasos adelante por eso no nos opondremos desde luego a la enmienda de transacción
pero señor becerra se ha dado un paso atrás con la enmienda de transacción muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

egun on guztiori mila esker tejeria andrea bueno en el pleno de control del pasado día siete interpelamos al gobierno a cerca de sus planes

y nuestra interpelación para un asunto tan importante al igual que la moción de hoy se hacían y se hacen con un talante constructivo

sino quién tiene la solución y qué puede aportar cada cual para que esa solución llegue a tiempo y recalco lo de que llegue a tiempo porque la situación actual de ess bilbao es más comprometida de lo que se está diciendo y en este punto conviene volver a recordar lo que es ess bilbao y lo que representa en términos económicos de empleo investigación

tenemos entre manos un proyecto para desarrollar tecnología puntera que emplea a casi setenta personas de alta cualificación y que tiene la oportunidad de formar parte de un proyecto europeo

es además un proyecto que se lanzó a bombo y platillo desde las más altas instancias políticas vascas y españolas en un momento de bonanza económica

y sin embargo una vez que la sede principal se quedó en suecia

y los desencuentros de diversa índole que han sucedido por otro han ido abocando al proyecto a una situación crítica casi al borde de la desaparición como he dicho

medalla de plata a la basura y es que a veces desde el ámbito político no somos conscientes de que detrás de las medallas las cintas y las inauguraciones que acompañan a todo nuevo proyecto también hay personas que están fiando su futuro

a que ese proyecto salga adelante a que ese proyecto les permita un desempeño profesional adecuado y un medio de vida digno y en este caso son sesenta y cinco personas

por eso mismo es importante no dirigir el debate hacia el pasado sino hacia el futuro y por eso mismo el planteamiento de elkarrekin podemos

sino en resaltar las ventajas para el empleo y la economía vasca

así que repetiré en este punto de mi discurso los factores que precisa un proyecto de estas características para poder llegar a buen fin decía el día siete uno un apoyo político

y en este sentido es cierto que urge que el gobierno central solicite su adhesión al consorcio europeo del ess y así

por mantener la sede en euskadi y por cerrar de una vez cuestiones importantes como el calendario de aportaciones económicas coincido con usted señor barrio que es fundamental

la segunda cuestión importante es que exista una financiación estable y sin sorpresas que permitan al consorcio poder cumplir con los hitos del proyecto y con los compromisos internacionales adquiridos

ni estrecheces financieras y en tercer lugar es preciso que exista un proyecto científico claro y realista que posibilite la colaboración entre la universidad del país vasco y el consorcio

pero que tenga en cuenta también tanto las capacidades del tejido empresarial local como los condicionantes específicos propios de un proyecto internacional como

y es evidente que los tres factores son necesarios pero que además son interdependientes

de apoyo político decidido si no existe financiación no existe financiación si no media un apoyo político suficiente y la lealtad institucional a que se refería el señor barrio y no puede haber un proyecto claro y realista sin unos apoyos institucionales y económicos que le otorguen por un lado el impulso inicial

científico y académico del país y eso es precisamente lo que

el convenio original contemplaba una financiación de ciento ochenta millónes de euros que posteriormente se quedó reducido a la mitad y desde dos mil trece no ha habido ninguna aportación económico pero sin embargo los hitos del proyecto a nivel europeo

de modo que el consorcio ha tenido que redefinir su modo de funcionar y que adaptarse a los recortes porque lo esencial en un proyecto de este tipo es cumplir a rajatabla los compromisos alcanzados en el ámbito internacional por lo tanto si no hay dinero habrá que revaluar los objetivos y tratar que el resultado final sea el mejor dentro de lo posible

con las cartas que tenemos ahora mismo habrá que hablar con el resto de jugadores y ver cómo reorganizar la partida

esa sería una actitud irresponsable e inmadura impropia de quienes tienen que regir los destinos de este país aún existen

y afectados por los recortes de las aportaciones públicas y el sector de la investigación y la ciencia es sin duda uno de ellos y el ess bilbao es un ejemplo palmario de ello

por lo tanto y aunque coincido con el señor barrio de que evidentemente esta moción

es un acuerdo suficiente que entendemos que debe ser el primer paso de una nueva etapa para ess bilbao y para la investigación vasca en el campo de la aceleración de partículas y porque deseamos que esta acuerdo permita también desbloquear la situación de incomunicación institucional que nos ha traído hasta aquí

objetivos tan importantes como el empleo el desarrollo tecnológico o la promoción del talento científico autóctono deben estar siempre y recalco la palabra siempre por encima de las diferencias políticas y personales milla esker

gracias presidenta buenos días decía el señor becerra que

mirar al futuro y yo creo que en este caso sí hay que conocer el relato de lo que ha ocurrido para tener bien dimensionada la situación y por qué vamos apoyar

de transacción que hemos firmado porque miren en la pasada legislatura se trató este asunto de la fuente de neutrones por espalación en diversas ocasiones

que han tenido lugar ni los posicionamientos al respecto de este proyecto

ha pasado por etapas de muchísima incertidumbre de forma que el dos de mayo de dos mil trece se aprobó por unanimidad en este pleno una enmienda

ess bilbao como infraestructura clave del entramado científico tecnológico de euskadi se instaba al gobierno vasco a reclamar al gobierno de españa

con respecto a esta infraestructura científico técnica singular

a aclarar con urgencia el equilibrio entre los esfuerzos a dedicar a la realización de una instalación autóctona y aquellos dirigidos

se destacaba la importancia del servicio que ess bilbao desde su comienzo

igualmente se destacaba y reconocía el papel que la upv estaba llamada a jugar en este importante ámbito científico tecnológico se respaldaba además una nueva presentación del proyecto básico de ess bilbao validado por la comisión asesora

en el que se abordaban y detallaban los objetivos generales y específicos la memoria técnica los planos presupuestos cronograma aparataje laboratorios instalaciones

a qué suena a qué suena lo que traemos hoy a lo que hemos estado hablando bueno como les decía dos de mayo de dos mil trece una iniciativa aprobada por unanimidad en esta cámara con posterioridad en octubre de dos mil trece unos meses después de esa iniciativa de haber sido aprobada con las comparecencias de los directores de

el director ejecutivo y el director científico en esa comparecencia

se explicó la evolución del proyecto su significado la importancia estratégica su impacto en la ciencia vasca su conexión con ess a be y en definitiva las capacidades desarrolladas hasta el momento

tanto burdo porque las comparecencias suelen ser extensas pero sí que se concluía de aquellas comparecencias que estando ante una oportunidad lo realizado hasta entonces era válido si se veía el peligro de no conservarse las dos cualidades fundamentales que el proyecto recogía en los estatutos uno su desarrollo como una instalación autónoma y que además sirviera

y se hablaba entonces de la necesidad fundamental de definir un proyecto no solo para dar servicio a suecia sino para lo que significaba de capacidad de desarrollo propio vasco

la participación española en el proyecto internacional hacía casi un mes se abrió una nueva etapa y se nos decía por el gobierno vasco que el proyecto

y que la participación española pasaba del diez por ciento al cinco por ciento con una contribución de noventa millónes de euros en lugar de los ciento ochenta millónes previstos en un principio y el reto era entonces desde el punto de vista científico y tecnológico que

de conocimiento en ciencias y tecnologías neutrónicas desarrollando equipos y sistemas que fuesen testados en los bancos de pruebas que había que construir y poner en marcha

que servirían tanto para la fuente europea como para otros proyectos

y esa es una de las claves de este asunto la decisión aquella para los socialistas vascos fue una decisión equivocada así lo manifestamos y así lo expresamos en su momento

con lo esperado en el proyecto original una posición que además desde el malestar volvimos a reiterar con posterioridad en varias ocasiones y lo y redefinido el proyecto en dos mil

eric ess en el que se ha acordado con los socios internacionales la participación del estado español de momento como socio y a día de hoy las incertidumbres siguen presentes lamentablemente

señor barrio porque los presupuestos del estado no han sido aprobados todavía y por el hecho de que no se haya suscrito todavía por el estado su adhesión

aunque hay una prórroga concedida como usted bien exponía no se han llegado a asumir las condiciones que requiere dicha adhesión y el gobierno vasco

hace unas semanas afirmaba que había trabajado incansablemente todo este tiempo para que se llevase a cabo la adscripción

y no como socio observador porque de esta forma no hay capacidad de asegurar la disponibilidad de paquetes de trabajo de interés científico y la única forma

para el periodo dos mil diecisiete dos mil veinticinco era que españa suscribiese

como socio fundador por eso lo planteamos en la enmienda que hemos transaccionado con el grupo nacionalistas vascos con el grupo elkarrekin podemos y que también apoyará

si tenemos en cuenta que los objetivos de este proyecto es que tenga un impacto positivo

en el desarrollo económico de euskadi que nos capacite para posicionarnos como referentes en la aceleración de partículas a nivel internacional si debieran

hacer mención o posicionarse también respecto a la preocupación del gobierno sobre el incumplimiento de los objetivos fundamentales de esta colaboración y yo quiero agradecer a elkarrekin podemos y también al partido popular que ha entendido que el tema de la upv de la universidad y la colaboración con ess bilbao y el hecho de la incidencia que este asunto puede tener

científica vasca sea realmente un tema que se haya acordado y hayamos podido trasladarlo a esa enmienda de transacción porque efectivamente es un problema entiende el gobierno vasco y que entendemos los partidos que sustentamos

el hecho de que no se haya dado hasta la fecha esa colaboración con la universidad del país vasco a mí no me parece baladí que el gobierno plantee

sustancial e importante lo contrario sería denunciable así lo entiendo yo

que habíamos planteado y que ahora también se recoge en la transacción debe servir para que las empresas vascas tengan capacidades y vayan creciendo en la aportación

porque es preocupante al menos a los socialistas vascos nos lo parece es preocupante que ess bilbao esté volcado en la realización de una labor más vinculada a la ingeniería que con el valor

y también es preocupante que no haya constancia de ningún incremento significativo

relacionada con la neutrónica en euskadi como consecuencia de las inversiones que se han realizado hasta el momento

vasca que la contribución de euskadi que nuestra aportación debe en primer lugar garantizar que las empresas vascas vayan a ser adjudicatarias de los contratos que promueve

pero hoy a día de hoy no hay garantías de eso y también creemos que se debe garantizar que los grupos de investigación vayan a tener un desarrollo en este ámbito más allá del periodo de construcción de la fuente de neutrones por espalación y tampoco hay garantías

la enmienda que hemos logrado transar porque se dan pasos señor carmelo barrio nosotros creemos que se dan pasos

al menos a día de hoy una enmienda por unanimidad adelante ante un proyecto de carácter internacional que sabemos que cualquier duda que se pueda plantear en ese ámbito puede suponer que dinamitemos el propio proyecto que por intentar hacer el bien con mucho voluntarismo

para la economía vasca para la ciencia vasca para la industria vasca y también para la universidad

por eso creo que haber podido exigir determinadas cuestiones como la colaboración con la universidad del país vasco haber conseguido también el hecho de la impronta

vasca y haber conseguido un acuerdo por unanimidad no va a ser ninguna cuestión baladí sino que daremos otro paso más

escaso o pequeño pero habrá sido un paso adelante que parece que es muy importante en los tiempos que corren y sobre todo ante las incógnitas que tiene en estos momentos planteada

quiera instar al parlamento o al gobierno de españa por echar balones fuera

pero es que esta es la realidad hartutako erabakia administrazio bien kontsentsuetan negoziazio baten ondorio izan zelako eta ados

bueno no puedo empezar

al señor latxaga el haber repetido hoy aquí mis palabras

una vez que usted las ha repetido creo que se han entendido mucho mejor y además las

su vigor pero bromas aparte vayamos al tema que nos ocupa

un proyecto que estaba llamado en su momento estuvo llamado a ser bandera o buque insignia de la ciencia y la tecnología vasca que en el caso de haberse materializado en su concepción inicial el haberse convertido en la sede central del proyecto europeo

sin lugar a dudas el proyecto científico tecnológico más importante de este país y que hoy no sé si decir hoy o por lo menos hasta ayer estaba a punto de terminar como el rosario de la aurora

al borde del precipicio esa es la situación a la que unos y otros han llevado

porque a raíz del acuerdo que hoy se va a suscribir en esta cámara por unanimidad entiendo

que han venido rodeando a esta cuestión argi dago gobernuek bi gobernuek ez dutela jakin

de cómo no gestionar un proyecto de esta naturaleza estamos llegando o hemos llegado a una situación que como decía espero que a partir de hoy viva un punto de inflexión y un cambio de tendencia en la que asistimos a un juego de faroles por parte de las administraciones

con partidas de dieciocho millónes que en realidad no son de dieciocho millónes sino que son de créditos al estilo de invito yo pero pagamos a medias en fin

de faroles y de no querer asumir con claridad responsabilidades que ha llevado al proyecto a una situación límite y tengo que decirlo con pena que estamos dando el espectáculo aunque no seamos algunos parte de los gobiernos concernidos y responsables pero como país estamos dando el espectáculo como decían en las familias bien entre comillas de antes estamos dando qué hablar

en las bases altas instancias de responsabilidad sobre este tipo de cuestiones incluso en la sede

espalación que se estarán alegrando de no haber otorgado al estado español el carácter de sede central y principal del proyecto

la gestión de una parte supeditada al proyecto muchísimo mayor que el proyecto en su globalidad

a saber si somos dignos de que se nos conceda la gestión

egon delako akordioa egon da podemos pedía básicamente cuatro cuestiones

hubiera un acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno del estado español para garantizar la financiación de este año y un segundo acuerdo para garantizar la financiación hasta el año dos mil veinticinco y que se revisaran determinadas cuestiones relacionadas con el proyecto

similares el partido popular se limitaba a pedir la entrada en el eric en este caso instando al gobierno vasco a que a su vez instara al gobierno español y en segundo lugar

pedía nuevamente la entrada en el eric y además añadía cuestiones que a nuestro entender también son importantes y que se han incorporado en el acuerdo final como la mejora de la colaboración con la universidad

gauzak argitzen dituelako porque todas las propuestas y las enmiendas entendían que era fundamental como así es que se entrara en este

modelo de gobernanza que se establece en europa para los proyectos y las infraestructuras científicas de gran calado porque eso es lo que nos va a dar la vía para luego poder atraer hacia bilbao

ese punto se recoge en segundo lugar una cuestión fundamental que también está muy relacionada porque la entrada supone que estén establecidas unas condiciones de financiación que den seriedad credibilidad y sostengan el proyecto

y efectivamente esa segunda cuestión también se recoge en el acuerdo al que hemos llegado y se va a establecer o se solicita que se establezcan

hasta el año dos mil veinticinco y un último apartado que también nos parece importante y desde el punto de vista de nuestro grupo no ha tenido que ser ninguna concesión a la negociación sino que asumimos como propio también

sea incluido es la cuestión que hace referencia a una mejor

universitario y de investigación y de la red vasca de ciencia y tecnología como en el ámbito de

para el desarrollo de la industria en el país y para ayudarla a avanzar en el desarrollo

tecnológico también por tanto una vez establecido este acuerdo como decía anteriormente esperamos que se constituya el punto de inflexión

que ha sido foco permanente de conflicto un proyecto que en realidad efectivamente era complejo y podía dar pie a problemas de gestión abundantes

por una falta de acuerdo estructural y por una mala gestión por parte de las administraciones implicadas a partir de ahora y con esta hoja de ruta que hoy establecemos entendemos que sería posible dar la vuelta a esta situación y poner en valor el proyecto

tiene gran potencial y que efectivamente puede aportar no solo en la generación de puestos de trabajo de alta cualificación sino como decía anteriormente convertirse en un elemento tractor

si todo el mundo está de acuerdo en cumplir lo que hoy hemos firmado efectivamente pasaríamos página y entraríamos a rentabilizar realmente económica pero también social y científicamente un proyecto que realmente

y pasar a ser una fuente de aportar soluciones a diferentes problemas de esta país hemos llegado al consenso no estamos sobrados en este país de centros de investigación y desarrollo tecnológico

creemos que es importante defenderlo creemos que es importante desarrollar ese potencial

la voluntad expresada por los grupos parlamentarios en el día de hoy para llegar a este acuerdo sea luego tenida en cuenta por los gobiernos y realmente este proyecto salga adelante tal y como se merece no quisiera finalizar sin reconocer además que

la actitud de los demás grupos para llegar a un acuerdo pero también la actitud del comité de empresa de ess bilbao

que creo que han realizado un trabajo de información y de contraste permanente con los grupos de esta cámara que ha facilitado mucho nuestra sensibilización

gracias presidenta sí también con brevedad señor becerra tiene razón hay

hacía al futuro en relación con esa cuestión y el futuro el futuro es adenda adecuación del convenio y financiación acuerdo del gobierno vasco con la secretaría de estado y en este momento es la secretaría del estado

pidiendo al gobierno vasco que porqué no se reformula el convenio que ese es el elemento fundamental este momento y es la callada por respuesta es decir en una situación de incomunicación pero es una situación de incomunicación unilateral

créame que eso es así por eso mismo ese primer punto es un punto desequilibrado es un punto desproporcionado y yo entiendo que el gobierno de españa oirá el llamamiento del parlamento vasco la instancia del parlamento vasco lo primero que hará será hablar por teléfono oye habéis instado eso estamos de acuerdo no modificamos el convenio no

por eso mismo en la insatisfacción o en la critica que podemos hacer

tendremos que dar ese voto de confianza a que el gobierno vasco

a que se entusiasme un poco porque visto el otro día la actuación tan triste

con uno de los elementos que puede ser tractor dinamizador de nuestra economía de nuestra ciencia de nuestra innovación visto el otro día el discurso tan triste de la señora consejera de la presidenta del consejo rector del ess bilbao eso es lo que nos hizo caer el alma a los pies

y la otra parte nos ha dado garantías y nos ha dicho que están deseando que se llegue a ese acuerdo a la firma de ese convenio pero tiene que haber dos no hacen si uno no quiere y en ese sentido ese es el elemento fundamental yo estoy de acuerdo con lo que la señora corcuera ha hecho

histórico y de situación y yo creo que lo bueno es decir independientemente

hay que actuar se ha garantizado por las administraciones de una manera o de otra

y efectivamente la secretaría de estado está comprometida con el proyecto y el gobierno vasco está raro

asustadizo en relación con ese tema y ese es el elemento fundamental

dependientemente de los problemas o independientemente de la valoración del compromiso económico presupuestario ya sabemos que estamos en un momento complicado pero el gobierno vasco esta raro

y muy asustadizo muy triste en este tema

en euskadi con el desarrollo que tiene que ver y claro que sí claro que sí

y con los acuerdos que haga falta con la universidad del país vasco y el resto de las universidades o centros

pero primero hay que comprometerse con él con el proyecto con la construcción con el desarrollo con la puesta en marcha con los cuarenta y cuatro y pico millónes de euros que hay que poner sobre la mesa en ese acuerdo al que la secretaria de estado de investigación desarrollo e innovación está dispuesta que lo ha dicho mil veces y el gobierno no contesta

en relación con esa cuestión claro que sí claro que es bueno que se acuerde con la universidad del país vasco

se va a producir cuando la colaboración sea la leal la normal la ordinaria por supuesto que sí es un camino a recorrer el de

científico de esas características con lo que puede ser lo mejor de la sociedad vasca y del resto del entorno y de las universidades españolas

para salir en algunos caso a la universidad del país vasco de algunas insuficiencias que tiene que sí que es una oportunidad para todos desde luego nuestras empresas también buena parte de nuestras empresas tecnológicas están perfectamente preparadas para colaborar con el proyecto

en las visitas que hemos tenido históricamente a la ess bilbao cuando hemos estado

científica con la dirección con los trabajadores con los ingenieros con los físicos con las físicas nos han dicho que efectivamente había empresas preparadas y en ese sentido

con el señor urrutia no voy a discutir está bien claro que él tiene que defender la posición

que claro que está presupuestado un crédito de compromiso para varios años le recuerdo señor urrutia que el gobierno vasco ha presupuestado dos euros

dos euros ya hablábamos el otro día para qué servían dos euros

de neutrones genéricos y en ese sentido yo creo que hay que ser un poco más serio en ese sentido pero bueno eso está así lo fundamental

podamos trabajar y desde luego

que no esté tan triste que se entusiasme no sé que no
se mueva en la desconfianza mesedez carmelo jauna amaitu mesedez

sí que creo que aquí no hay buenos y malos incluso si me apura yo diría que no hay buenos casi todos han actuado de forma incorrecta en algún momento

dice con toda la razón la señora corcuera que andamos con esto desde dos mil trece

se ha trabajado incansablemente pues tampoco tampoco yo diría que

eskaerak egiteko momentua baizik eta eskaintzak egiteko momentua be bai no es el momento solamente de pedir sino también de ofrecer

de un proyecto común que como también ha dicho el señor urrutia efectivamente nació con dos objetivos

pero evidentemente existían esos dos objetivos y efectivamente uno de los objetivos tendría que ser trabajar codo a codo con la industria vasca y también con la universidad del país vasco

se hizo además en los primeros años se hizo de forma fluida y aún se hace hay equipos de la universidad del país vasco trabajando con ess bilbao menos que antes es cierto pero los hay también la industria vasca trabaja con ess bilbao el setenta y siete por ciento de los contratos

por qué no se trabaja más bueno pues evidentemente porque no hay dinero cuando a un proyecto se le reduce la mitad del presupuesto se tiene que centrar de los dos objetivos en el objetivo que es ineludible

y hay que entender que tanto el gobierno central como el gobierno vasco pretenden una cosa que es la cuadratura del círculo pretenden igual que en sanidad

hacer lo mismo con la mitad pero eso en ciencia avanzada es sencillamente imposible los recortes siempre inciden en la calidad del resultado final sí o sí

y rehacer reevaluar los objetivos en la medida en que tengamos dinero eta eskertu nahi diot eh bilduri ze

herri helburu bat dela esto es un objetivo de país porque

necesitamos apoyar este proyecto porque es el único proyecto de ámbito europeo que ahora mismo tiene su sede en el país vasco y si algún día queremos tener una fuente compacta de neutrones que por cierto cuesta doscientos millónes de euros y habría que ponerlos

de ess bilbao pues evidentemente lo que no vamos a conseguir es ser

será mayúsculo y por eso yo entiendo que el acuerdo al que hemos llegado sin ser el mejor y sin ser el óptimo

para que a partir de ahora ess bilbao tenga una nueva etapa más ilusionante quizás como dice el señor barrio pero desde luego

que desde luego hasta ahora no se ha visto muchas gracias eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

sin duda la financiación en cualquier proyecto es importante y en este caso

pero esa financiación debe ser adecuada a los fines y a los objetivos que se pretenden y está claro que en este proyecto hay asuntos que deben aclararse y que deben despejarse y quedar medianamente claros si realmente nos comprometemos a ser socios fundadores de eric como es

que se ha demostrado porque hemos firmado esa enmienda y es preocupante que la producción científica sea escasa en euskadi en relación con otros centros de investigación locales

en la aportación de equipos y en general en la relación con nuestro tejido empresarial y también es cierto

pero a mí sí me parecía importante dejar en evidencia que este proyecto no ha tenido una trayectoria ni pacífica ni simple

como así también lo dijimos los socialistas a través de nuestra compañera isabel celaá por lo menos sigue contando con un amplio apoyo político en esta cámara lo decía al principio de mi intervención aquí lo principal es actuar con rigor con prudencia pero tener también muy claros los objetivos a los que pretendemos llegar con esta inversión

en su origen este proyecto y mire señor barrio cuando habla usted de

mi compañera isabel celaá no habrá visto usted una mujer más entusiasta con este proyecto creo que en todos los que hemos estado en la anterior legislatura y en esta pero es verdad que cada uno no puede tener el estado de ánimo que usted pretende entonces claro acabaremos todos yendo a terapia

creo que a los proyectos se les encuentra el entusiasmo creyendo en ellos de verdad

más alegres y otros igual un poco menos alegres pero yo creo que lo importante aquí es ser rigurosos y creo que si el gobierno vasco

y hemos sido capaces de recogerlos en una enmienda transaccional eso es lo que vale aunque

ni la consejera de educación ni la consejera de desarrollo económico e infraestructuras no podemos pretender que los demás hagan lo que igual nosotros no hemos tenido porque tampoco

no todos los grupos políticos no todo el mundo manifestó ese entusiasmo que hoy usted aquí sí ha planteado en la tribuna y fíjese cómo será de entusiasta la cosa que hasta ha firmado la enmienda un grupo que no era enmendante

hemos solventado el entuerto así que yo creo que lo principal es que los grupos que hemos

esa enmienda que hemos logrado sacar entre todos adelante creo que ese es el verdadero entusiasmo

que no desilusionemos y que las expectativas que vamos generando y que vamos creando se consoliden porque además

en realidades porque el futuro no está no acaba en el dos mil veinticinco ni con

explicitada de dos mil diecisiete a dos mil veinticinco ahí no debe de acabar ese proyecto el proyecto para euskadi va mucho más adelante que en el dos mil veinticinco y debe ser ese proyecto de futuro para que realmente esa inversión que hacemos todos en unos momentos también delicados para la economía aunque vaya saliendo adelante debe ser una inversión productiva y eficaz

pero también para la universidad y la investigación en euskadi yo creo que ese es

el objetivo de todos yo no considero que cuando hay problemas entre las administraciones la mejor manera de conseguir

entre administraciones sea planteando determinadas iniciativas porque yo estoy convencida de que los problemas van a seguir aunque

dado por buena una iniciativa por unanimidad los problemas seguirán existiendo entre ambas administraciones entre administración del estado y la administración del gobierno vasco pero hay que actuar

cuando ha habido desconfianzas por parte del gobierno vasco respecto a la administración del estado

impulsando la colaboración interadministraciones ahora pasa lo mismo no se puede intentar ridiculizar el hecho de que haya

en cada departamento cuando sabe usted perfectamente que lo importante y lo sustancial y lo esencial es que realmente existan esas partidas y las partidas existen

que no han aprobado los presupuestos es que no hay aprobación de presupuestos generales del estado a día de hoy jueves no la hay y por lo tanto no demos por avanzado cosas que están todavía quizás en el limbo o en las incertidumbres

la verdad es que ha dicho unas cuantas cosas que oiga cuando menos me provoca

que en base al primer punto de su enmienda inicial hablaba del plazo de un mes para acordar con el gobierno de españa la tramitación de la solicitud de ingreso de españa como miembro del eric esto está acordado es que está acordado

está acordado el doce de junio de dos mil quince en el consejo rector de la ess bilbao

es competencia del estado y en todo caso esperamos que asuma su responsabilidad

los compromisos están tomados en ese mismo acuerdo primero el ingreso en la eric ess como socio fundador y luego todo lo que usted hablaba

el pacto la financiación etcétera etcétera es que la reflexión que me lleva es cuál es el empeño

del consejo rector de la ess bilbao no no me hagas así porque

que primeramente era el ingreso en el consorcio europeo y después venía todo lo demás y yo creo que la enmienda de transacción que se ha aprobado va en ese sentido

pero lo que se ha hecho es incluir una propuesta en los presupuestos generales del estado una autorización para que ess bilbao

en este sentido además dicho endeudamiento debiera ser acordado y aprobado por el consejo rector de ess bilbao lo cual en todo caso sería un acuerdo de endeudamiento de ambas administraciones no solamente de la administración general del estado

por otro lado la información presentada por el ministerio de hacienda en el congreso de los diputados del presupuesto del estado para el dos mil diecisiete aparecen unas cantidades para los años dos mil dieciocho dos mil diecinueve y dos mil veinte

para ello debiera darse un acto administrativo que corrobora dicho compromiso firme de aportación y este acto no se ha dado por lo tanto vamos a lo fundamental y lo fundamental el elemento fundamental está en la entrada de españa en el consorcio europeo en la materia habla usted de que el gobierno de españa está cumpliendo sus compromisos desde cuándo

dos meses después de ese acuerdo de doce de junio de dos mil quince dos meses después el gobierno vasco se entera por el boletín oficial de las comunidades europeas

observador y no como socio fundador desde cuándo cumple sus compromisos

el ministerio de economía presenta en el congreso de los diputados el compromiso de entrar como socio fundador y pone como tope máximo septiembre de dos mil dieciséis y septiembre de dos mil dieciséis fue hace siete meses y seguimos en la misma situación

mire podrá hacer usted el chiste del presupuesto del gobierno vasco de los dos euros

la verdad es de ignorantes pues las partidas sin dotar convenientemente en un presupuesto a la espera de acontecimientos se dotan con un euro para mantenerlas abiertas y además tienen un carácter plurianual tanto en el departamento de educación como en el de promoción económica

si todo el mundo tiene el compromiso de la señora uriarte o si todo el mundo hubiera tenido el compromiso de la señora uriarte y de la señora tapia esto no hubiera llegado al parlamento y no estaríamos hoy debatiendo

pues yo creo que no se ha leído usted la trascripción de la interpelación lo que le contestó porque a mí me ha parecido clarificador

el gobierno español ha bajado el presupuesto en innovación cerca de un treinta y cinco por ciento

gran parte a crédito eso en los años en los que ustedes nos han machacado diciendo la gran bonanza económica

y ya vemos ya vemos cómo autorizan ustedes las condiciones de financiación en el caso de ess bilbao por lo tanto no venga aquí a poner en solfa el compromiso del gobierno en esta materia señor becerra muy brevemente hablaba usted de medallas de que la medalla de oro

no la conseguimos y entonces queríamos echar la medalla de plata a la basura yo

que con este compromiso empecemos cuando menos a conseguir la medalla de bronce

les valen para todo pero yo creo que realmente ha practicado el recorte el que realmente ha practicado el recorte es el gobierno de españa

de que cumpla con sus compromisos para que nosotros podamos dotar económicamente y debidamente las partidas que tenemos abiertas

decidido y sin fisuras eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

nuestro objetivo con el debate de hoy con la resolución a la que hemos

era cerrar filas en esta cámara para garantizar el futuro del proyecto de ess bilbao y cuando decíamos garantizar el futuro

no estaba y sigue sin estar garantizado hace apenas tres meses

del proyecto de ess bilbao preguntándome si el hecho de que este proyecto

implicaba la desaparición del mismo y la extinción de los contratos es decir desde hace tres meses de lo que se está hablando entre los trabajadores y trabajadoras del proyectos es de si va a seguir en pie si va a seguir abierto si va a seguir en funcionamiento o si va a desaparecer estamos en esa situación cuando antes decía que estábamos ante un juego de faroles entre los gobiernos responsables

en la cual parece que tanto el gobierno vasco como el gobierno central están haciendo una de esas carreras de coches que se ven en las películas hacia el abismo a ver quién frena primero pero claro el coche que va hacia el abismo es el coche de ess bilbao y

hay que reconsiderar la cuestión y no podemos ponernos ahora a decir bueno pon tú el dinero primero no ponlo tú cuando tú lo pongas lo pongo yo no ponlo tú oiga vamos a ser serios y yo creo que el acuerdo al que se ha llegado hoy

para entrar en un proceso de resolución definitivo porque lo que tiene que pasar

a ser una oportunidad y es indiscutible que a día de hoy para las administraciones públicas da la impresión de que ess bilbao ha venido siendo hasta ahora un marrón cuando es un campo con un potencial extremadamente alto lehen aipatu den moduan horrelako oso proiektu

gure herrietan la aceleración de partículas la neutrónica son una oportunidad

de ingeniería prácticos pero también para crear una escuela en esos ámbitos en nuestro país

de partículas en europa tienen una demanda de uso que triplica la oferta es decir es una funcionalidad que tiene una importante demanda que tiene un gran futuro

no se pueden desarrollar de la nada y ya que tenemos entre manos este proyecto vamos a optimizarlo y vamos a sacar todo el potencial que tiene

no nos vamos a quedar lamentándonos de lo que pudo haber sido y no fue que evidentemente

en lo que puede llegar a ser y en ese sentido apelamos a la responsabilidad

de las administraciones y de los gobiernos implicados es verdad que el gobierno español se caracteriza decía antes que el señor becerra mete lo de los recortes por todos los lados

descomunal ha sido uno de los campos que más ha sufrido y evidentemente eso nos lleva a pensar que no ha habido un exceso tampoco de entusiasmo por parte del gobierno central

el señor barrio cuando dice que por parte del gobierno vasco entusiasmo ninguno da la impresión que es un proyecto que les ha quemado entre las manos y cuando la señora describía por ejemplo la falta de relación con la universidad o con el tejido empresarial parece que lo hacía en calidad de observadora en calidad de notario en calidad de periodista que está analizando un fenómeno ajeno a su responsabilidad cuando ella es en estos momentos la persona que ocupa la máxima responsabilidad en el consejo rector es decir ella es la jefa

entonces no se queje de lo que están haciendo sino trabaje y yo

resultados pero por lo menos le pido que plantee vías de resolución de estos problemas si se trabaja poco con la industria vasca que se trabaje más si se trabaja poco en la universidad

aquí no solo es importante generar una serie de proyectos para la sede lund sino que es mucho más importante que sirva de elemento tractor

en este país en ese sentido tiene usted razón en reclamar una mayor implicación pero también tiene que entender que es usted una de las personas con una mayor responsabilidad

hemos planteado como decía anteriormente una hoja de ruta que va a permitir a los dos gobiernos cumplir sus responsabilidades si realmente tienen intención de cumplirlas se ha eliminado cualquier referencia que pudiera resultar ofensiva o que realizara una carga crítica hacia uno u otro de los gobiernos para que evidentemente no se

y ahí lo tienen ustedes ahí tienen ustedes una hoja de ruta entrada en el eric

y mejora de la interrelación con el tejido universitario y empresarial tienen la hoja de ruta ahora son los gobiernos los que están emplazados a desarrollarla y llenarla de contenido

una moción derivada de la publicación del documento de criterios de lanbide lo primero que me gustaría decir es que de un modo u otro y tras la interpelación del día siete todas hemos dado un paso adelante y con el acuerdo al que parece que hemos llegado parece que ha sido un poco in extremis espero que estemos dando por el buen cumplimiento de la normativa en beneficio de la ciudadanía la publicación de los criterios que desde el año dos mil trece se vienen utilizando sin conocimiento de la ciudadanía

pero creemos que esto no debe acabar aquí y creemos que no debe acabar aquí porque la publicación por sí sola no es suficiente ya que entre enero del año

de las cuales solo en el año dos mil dieciséis hubo más de veintiséis mil extinciones y suspensiones

han sido por incumplimiento de obligaciones el documento de criterios que se viene aplicando desde el año dos mil catorce al menos que sepamos planteaba obligaciones

hace un momento y que además en el documento publicado la noche del pasado seis de abril han desaparecido son obligaciones

seguro han dejado a muchas personas sin sustento no las obligaciones perdón sino el incumplimiento de las mismas concretamente por poner un ejemplo cualquiera más de setecientos de los procedimientos de cobros indebidos realizados en el año dos mil dieciséis responden a la obligación de no salir de la comunidad autónoma

sin conocimiento de la ciudadanía y bajo la cláusula legal de tener que estar permanentemente disponible para el empleo esto como vemos interpretación pero vemos también que en el nuevo documento de criterios esta interpretación ha desaparecido y ahora nos preguntamos acaso sí alguien se marcha a murcia a buscar trabajo deja de estar disponible para el empleo

va a perder su condición de residente en euskadi acaso se le va a aplicar una medida que ya no existe ni es pública o no bueno nosotras consideramos sobre todo como ya comente el

porque ya les leía de la página treinta y ocho del documento de criterios de diciembre de dos mil catorce cuando claramente se establece

con lo que pueden ver esto no habla de la ley habla del documento de criterios

es importante es de obligada aplicación y por lo tanto lo era su contenido y por lo tanto es de necesidad publicarlo hay que reconocer

se ha vulnerado un derecho reconocido en la normativa vigente y también en el marco jurídico del país vasco se ha vulnerado

y por lo tanto la moción de hoy es más que necesaria

no voy a dejar de pensar en quienes no han visto garantizados estos derechos ni protegida su situación en los años pasados y creo que ninguna de nosotras debería hacerlo y lo creo

creo que con la transacción de hoy damos un paso adelante en este sentido y creo que además es un paso importante porque viene con acuerdo de toda la cámara no obstante

una idea de por qué esto que estoy diciendo es tan importante les voy a poner algunos ejemplos de cambios que ha habido entre el documento de dos mil catorce y el documento de dos mil diecisiete

suponen la aplicación o no de obligaciones a la población perceptora del documento de dos mil catorce desaparecen cosas como por ejemplo la

o ausencias temporales desaparece también lo relativo a gastos e ingresos injustificados antes y después de solicitar la rgi

no de cobertura de necesidades básicas podría tener una suspensión por incumplimiento desaparecen también

desaparecen también las aclaraciones sobre unidades de convivencia que establecían que las personas no podían compartir cuentas de banco con otras que no fueran parte de su unidad de convivencia o no podían comprar una casa con un amigo o amiga desaparecen estas cuestiones

las interpretaciones que se pueden hacer de la normativa no obstante

considero que estas medidas que han desaparecido no eran medidas justas pero sobre todo no eran medidas que contemplara la ley y creo que gracias a la

damos un paso adelante para un cumplimiento mejor de la ley y sobre todo para evitar que cosas como estas se vuelvan a repetir en el futuro es importante no dejar al albedrío de todas las personas que trabajan en lanbide la aplicación de una norma que ya viene dándose durante años de una norma o de un documento que no es norma porque sabemos

personalmente tengo miedo y tal vez por eso insisto

volver al tiempo de confusión y de interpretaciones libres de una normativa que hace ya mucho tiempo que precisa de un reglamento actualizado

esperemos que con la reforma que viene esto también se pueda arreglar y entendemos también que por lo tanto esta moción tiene el sentido y paso a explicar el contenido de la misma entendemos que tiene sentido porque este documento de criterios tiene mucha importancia a la hora de gestionar la renta de garantía de ingresos y entendemos que tiene sentido porque lanbide apuesta por ser transparente por mejorar la gestión por tener certificaciones de calidad es indispensable que en un plazo breve

también creemos que es preciso continuar adelante con esta moción porque es preciso aplicar la normativa y blindar de una vez la seguridad jurídica de las personas perceptoras

y dado lo que comentaba la consejera en la comparecencia de la semana pasada que como este es un documento vivo y va a estar sujeto a cambios o modificaciones habituales

y por lo tanto publicando esta moción o esta transacción estamos contribuyendo a garantizar esa publicidad y por último los cambios que provoca en el ejercicio del derecho este documento creemos que es importante que conste también en la transacción la garantía de aplicación de los mismos desde la fecha de publicación porque esto es lo que establece la normativa y porque es de justicia que se haga así porque ya está bien de poner siempre por delante

de mayor importancia la premisa de que las personas que están en situación de pobreza

o no cumplen la ley porque no quieren porque ya está bien de poner por delante la persecución y la revisión de lo mal hecho y no la protección y las oportunidades de construir

porque entendemos que nadie merece que se cambien las reglas del juego en medio de un partido y menos si esas reglas del juego me dejan fuera sin saber por qué y ahora me podrían volver a incluir pero nadie me lo cuenta ni me facilita que lo entienda

en parte creemos también que la sostenibilidad del sistema ha de sustentarse sin duda en la aplicación de la ley pero en la aplicación

de cuestionamiento creemos que el control y que las circulares o los documentos de criterios tienen que enfocarse y utilizarse como herramientas que son pero no pueden ni deben ser el fin del sistema o una excusa

valga generemos justicia apostemos por la solidaridad apostemos también porque la ciudadanía tenga una red sobre la que sostenerse no una

aurkeztutako testuarekin esta moción viene de una interpelación de podemos

de las instrucciones del documento que contiene mejor dicho

que se siguen en lanbide en la tramitación y aplicación de la normativa que regula la renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda

según ya se dejó constancia cuando se sustanció dicha interpelación

e instrucciones han sido recientemente publicados en la página web y a raíz de entender el grupo de elkarrekin podemos que había algunas

pero quiero decir que en aras a la seguridad jurídica está bien recordar algunas cuestiones pero solo faltaría que los documentos que se publican en las páginas

porque si no mal andaríamos también quisiera recordarle señora guanche

en cualquier caso aquí hay un principio de jerarquía normativa que rige tenemos una ley vigente la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social tenemos una normativa de desarrollo de dicha ley una serie de decretos y por lo tanto lo que rige es la normativa al margen de que haya unos criterios para interpretar cómo se aplica la normativa

previstas en la legislación vigente en ese sentido compartimos

tienen que ser claros en aras a un ejercicio de absoluta transparencia y es fundamental que la ciudadanía conozca estos criterios por eso nosotros en el primer párrafo que introducíamos en nuestra enmienda hablábamos de los conceptos que se contemplaban en el proyecto de ley de transparencia

documento normativa sean claros comprensibles accesibles para todos de lectura fácil y finalmente

son los calificativos que se han incorporado y por lo tanto nos damos por satisfechos otro de los puntos que nos parece interesante que es lo que nosotros recogíamos en nuestro primer punto

dicho documento a las modificaciones que se puedan hacer y en un segundo párrafo pero tengo que decir que también al final hemos de alguna forma

se recoja en el texto porque tiene que ver de una forma colateral

a la modificación que se pueda sustanciar en relación a la normativa que regula el sistema de protección en euskadi nosotros presentamos ya una iniciativa en relación a esa iniciativa se produjo un acuerdo en la propia interpelación en la contestación de la consejera se dijo que el quince de mayo se traería dicho informe en relación a las modificaciones en la normativa de la ley de garantía de ingresos y por lo tanto pues estaremos a la espera en qué sentido dichas modificaciones y bueno todo el mundo sabe creo que la posición del partido popular es conocida cuál es la defensa que nosotros hacemos de la línea en la que tienen que ir dichas modificaciones pero no por capricho sino por entender que hay unos déficits

que corregir los déficits y las deficiencias que presenta lanbide como servicio vasco de empleo para ponerlo definitivamente al servicio de la empleabilidad pero como entiendo que el objeto de la iniciativa era un objeto muy concreto sí que es cierto que

la expresión debidamente en el objetivo que al final se ha alcanzado en el acuerdo de transacción pero entiendo

es algo que está bien que lo recordemos pero también creo que de alguna forma puede ser redundante y por lo tanto no nos vamos

seguridad jurídica sí y sobre todo también señora guanche recordar el principio de jerarquía normativa está muy bien todo esto pero aquí hay una ley

unas obligaciones para aquellas personas que reúnen los requisitos y perciben las ayudas sociales nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

muchas gracias presidenta señorías hoy debatimos en este punto de este pleno una moción consecuencia de interpelación presentada por el grupo elkarrekin podemos

vasco de empleo lanbide de publicar los criterios de tramitación de la renta de garantía de ingresos

señalar que este compromiso lo bueno es que ya se ha cumplido antes de debatir hoy la presente moción mi grupo parlamentario fue el que más se preocupó en esta materia en la anterior legislatura

de proceder a actualizar los criterios de tramitación de la renta de garantía el gobierno vasco con fecha de tres de mayo en una respuesta efectuada a mi grupo parlamentario los socialistas vascos referente a la tramitación de la renta de garantía de ingresos el consejero el señor toña señalaba que estaba procediendo a una revisión de los criterios de lanbide

que dicha revisión se realizaría en los siguientes meses y se publicarían en el primer semestre de dos mil dieciséis en la página web

fueran conocidos por toda la ciudadanía dicha publicación no obstante se retrasó pero se ha efectuado y se ha llevado a cabo

por lo que esta iniciativa una vez que llegamos a esta moción ya está cumplida sin embargo nosotros creíamos que se podía aprovechar este momento para ir un poquito más allá y hacer algo más su publicación la publicación de estos criterios creemos que es positiva para los ciudadanos y ciudadanas del país vasco se ha publicado en su web

es lo que se venía demandando al gobierno vasco desde la anterior legislatura

luego en las diferentes oficinas de lanbide a la hora de tramitar los expedientes de la rgi y además el ciudadano puede ver y conocer cuáles van a ser los criterios que se le van a aplicar a la hora de tramitar sus expedientes

a la que he hecho referencia interpuse en el pleno del siete de febrero del dos mil catorce una interpelación al gobierno relativa a las recomendaciones del ararteko

vasco de empleo sobre la falta de motivación en las resoluciones de lanbide a la hora de denegar la renta de garantía de ingresos a los demandantes ello en base a una recomendación

que diga con claridad porque desestimaba cada demanda por ello el ararteko remitió una serie de recomendaciones al servicio vasco de empleo redujera sus recondujera sus actuaciones en esta materia con el fin de evitar una indefensión de los ciudadanos que necesitan saber cuáles son las motivaciones a la hora de realizar esas resoluciones negativas de que quieran recurrir contra las mismas existe una obligación legal del procedimiento administrativo de motivar las resoluciones limitadoras del derecho donde tienen que figurar los hechos que causan esa decisión las normas aplicables al caso en concreto y los fundamentos de derecho y dicha obligación

en la propia constitución española en su artículo veinticuatro y ciento tres también solicite la comparecencia del ararteko para explicar sus resolución ante la comisión de empleo políticas sociales y vivienda y gracias a ello hubo un compromiso del gobierno vasco de mejorar

y se hizo es por ello por lo que mi grupo parlamentario considera que

es muy importante para que el ciudadano pueda recurrir ante la delegación pero además

que unifiquen las resoluciones de lanbide para que así estos sean conocidos por todos los afectados ahora bien lo que sí ha de haber es una seguridad jurídica

inicialmente por el grupo elkarrekin podemos la señora guanche quería que unos criterios para resoluciones recientemente revisados por lanbide se convirtieran casi ley y se olvida de que unos criterios ya sean interpretativos o aplicativos no pueden ser confundidos con la normativa que regula la materia esos criterios se pueden variar con mayor facilidad

y va a seguir siendo así siempre pero además intentando supongo mejorar la situación lo que proponía conseguiría el efecto contrario por qué lo digo porque quería revisar todos los procedimientos realizados desde diciembre del dos mil catorce hasta

cuando se publican los nuevos criterios en la página web eso qué es lo que generaría

lo que no procede es que se lleve a cabo una revisión de todas las resoluciones que se han podido llevar a cabo en los últimos tres años porque eso no se hace ni cuando se vuelve

elaborar y se aprueba una nueva ley una nueva ley puede recoger cosas que nada tenían que ver con la ley anterior y eso no supone que per se

aplicando la ley anterior ni tampoco los jueces cuando han hecho sus sentencias cuando sale una nueva ley se ponen a revisar todas las sentencias que han hecho por aplicación de una normativa anterior y eso es lo que nosotros lo que se llama seguridad jurídica en nuestro sistema que hay que mantener

lo que pretendían era una suspensión una revisión de

por eso creemos que la enmienda transaccional firmada es buena porque recoge cosas

cosas lógicas y cosas que además mejoran una vez que ya se ha publicado en la web que ya se ha cumplido además el objetivo que se pretendía con esta interpelación

que se aplique a dicho documento en un plazo de tres meses los criterios de lectura fácil a fin de que la interpretación de los mismos sea homogénea

en segundo lugar se fija también en que se aplique correctamente la normativa existente con un cumplimiento de plazos y con la motivación de los actos administrativos para que

con el fin de implementar y mejorar la seguridad jurídica de los mismos en tercer lugar publicar todas las modificaciones que en el futuro pudieran contener este documento para que sigan siendo conocidas por todos los ciudadanos y garantizar la aplicación de los criterios de interpretación contenidos en dicho

por todos pero bueno está ahí creo que la publicación de los criterios que se van a aplicar por lanbide está realizado ya la inclusión de criterios de lectura fácil para una mejor comprensión

en plazo y la motivación clara de los mismos es buena se mejora mucho con esta enmienda transaccional se dan pasitos

que se ha aprovechado para incluir alguna cosa más y luego ya en mayo el departamento de empleo y políticas sociales va a traer como se ha comprometido me imagino el informe diagnóstico específico de todos los aspectos relativos a la

consejera la señora artolazabal en su intervención del otro día del siete de abril ya manifestó que sí serían presentados en breve aquí es por eso por lo que nosotros hemos firmado esta enmienda transaccional yo creo que sirve para dar

hacia adelante pero pasos sensatos pasos que garantizan una seguridad jurídica y que pueden beneficiar en cuanto a transparencia

positivo nada más y muchas gracias eskerrik asko

la jerarquía normativa estando en lo alto de la pirámide la ley

reglamento que no es más que el desarrollo de aquella y en un rango inferior a las dos anteriores

que sirven para aclarar y facilitar la aplicación tanto de la ley como del reglamento y que siempre y en todo caso han de respetar las normas de rango superior

además existen otras posibilidades para determinar cómo actúa un órgano múltiple como es lanbide para lo cual

cuyo objetivo es ordenar la manera de trabajar o atender determinada circunstancia presente o futura

para unificar interpretaciones y para que la respuesta a las personas administradas sean

de esta forma con la publicación de dichos criterios la ciudadanía tiene clara la interpretación que se dará a los supuestas en la misma contemplados y en el improbable caso

podrá ser exigido su cumplimiento por lo tanto objetivo cumplido entendemos de lo que usted pretendía con su iniciativa original a día de hoy habida cuenta de la iniciativa aprobada por el parlamento instando al gobierno vasco a proceder a modificar la

compromiso que vence a mediados del próximo mes de mayo lo que corresponde a nuestro juicio es aplicar correctamente lo existente con cumplimiento de plazos

todo ello con un lenguaje claro y entendible para que los administrados puedan ejercer todos los derechos que les asisten

firmada además su interpelación de la que trae causa la moción de hoy exigía la publicación de los criterios sobre tramitación de la rgi y ahora en el momento este de la moción que dichos criterios

un montón de cosas distintas a la publicación de los criterios que fue el objeto de la interpelación bestalde

hablado en privado ni desde el punto de vista jurídico ni desde un prisma práctico la revisión de oficio que usted solicita lo único que genera es incertidumbre jurídica siguiendo con la jerarquía normativa

nueva con criterios artículos distintos a la normativa previa en vigor no supone la adecuación de los supuestos de hechos anteriores a la nueva normativa aprobada de hecho

la irretroactividad de las leyes por lo tanto exactamente lo mismo ocurre con los criterios

además creemos que es el momento de avanzar de mejorar en el funcionamiento de lanbide y de reforzar el sistema

al gobierno esta retroactividad que se pide podría volver a desbordar el funcionamiento de lanbide y lo que es más importante crearía inseguridad jurídica

ezin gara bat etorri guanche andrearen mozioaren inguruan azaldutako hierarkia normatiboagatik baita en cuanto a la enmienda del partido popular a nuestro entender el punto dos no se circunscribe específicamente al asunto que nos ocupa no habla más de la postura del partido popular

sobre la supuesta ineficacia de lanbide a la que siempre suelen hacer mención a pesar

en foros tanto estatales como europeos eta amaitzeko

se pide el cumplimiento de lo que ya está haciendo el gobierno vasco porque estamos convencidos que dicha publicación redundará

siendo más homogéneo y porque además aporta seguridad jurídica a la ciudadanía que podrá servirse de un documento público para basar sus eventuales desacuerdos y o recursos se le da un plazo de tres meses al gobierno vasco para que el documento de criterios se adapte a estándares de lectura fácil irizpide hauek

de vuelta se ve que esta mañana correr es el tema porque está siendo todo como un poco acelerado señora garrido el texto ha mejorado por eso hemos llegado todos a un acuerdo y por eso lo hemos firmado y en eso estamos de acuerdo yo le quiero compartir tanto a usted como al resto

que han hecho mención a mi cambio de posición

los objetivos originales de la moción que presentábamos después de que ya se hubieran publicado los criterios nosotras pretendíamos que se cumpliera la ley en materia

y también lo que pretendíamos era como dije el día siete de abril en esta cámara que todas esas personas que han tenido sufrir un montón de suspensiones por criterios que ahora han desaparecido se vieran reparadas tal vez no hemos sido lo más

a la justificación jurídica yo no soy abogada no pretendo serlo no obstante tendré más cuidado de ahora en adelante y no les voy a engañar a ninguna

pero soy capaz de poner por delante lo que va a beneficiar a la ciudadanía

repetir digo yo digo nuestro grupo de elkarrekin podemos creo y vuelvo a traer aquí que esto es un paso adelante y que es un paso

sé que algunas de ustedes han hecho referencia a la redundancia de nombrar la seguridad jurídica o nombrar en la enmienda de transacción que se pusieran algunas de las cuestiones que hemos mantenido

sabemos que desde diciembre de dos mil catorce se está vulnerando el derecho

su derecho a la información y su seguridad jurídica sabemos que no queremos que esto se siga repitiendo y por lo tanto insistimos aun a riesgo de ser redundantes también

claramente el ararteko que estos criterios muchas veces se han utilizado casi como único elemento de interpretación o de consulta más allá de la propia normativa yo conozco bien la rgi conozco bien la normativa porque llevo años asesorando a personas

de quienes les aplican una obligación que no conocen porque no consta en ninguna parte conozco bien el drama de que a una familia que no tiene más ingresos que la rgi le vengan

por haber salido de la cae sin saber que eso estaba prohibido y por eso insisto y por eso hablo desde las tripas y por eso tal vez no soy todo lo correcta que debería ser

esta proposición porque sé que los criterios no me gustan y no es algo que creo que a ninguna de ustedes les sorprenda no me gustan porque juzgan y porque dan por hecho

diciendo que estos criterios no funcionan no están bien pero es que además deben ser públicos y además deben de dotar de seguridad a la ciudadanía

es un ejemplo más de ello barren para casa parece que pusieran por delante la capacidad de ahorrar presupuesto la capacidad de hacer valer la ley y eso me parece preocupante no me atrevo a firmarlo ni a decir

pero desde luego que lo vamos a hacer no tengan duda de ello insisto en que ha habido muchas suspensiones por incumplimiento de obligaciones insisto en que solo eso justifica

pido disculpas si ha habido algo que no hemos hecho con la corrección que se debiera y procuraremos mejorar en el futuro al igual que espero que haga este gobierno no creando instrumentos que se inventen la normativa y no la cumplan eskerrik asko

bueno pues efectivamente gracias señora presidenta yo sí creo señora guanche que el acuerdo ha posibilitado mejorar

su iniciativa original tiene que reconocerlo porque desde luego el acuerdo alcanzado no tiene nada que ver con alguna de las pretensiones que usted había plasmado en su texto original es más si hubiera mantenido el texto original tal y como lo teníais en sus reivindicaciones que era la posición que mantenía

en entender cuál era el mínimo común denominador en relación a esta iniciativa como lo hemos hecho los demás y obviamente el grupo proponente que haya hecho posible un acuerdo

que está muy bien repetirlas pero que va de suyo que la administración cumpla una serie de principios al publicar

públicos yo creo que también además este acuerdo ha permitido subsanar incluso algunas deficiencias que usted tenía en su texto original

texto que se apliquen criterios claros comprensibles entendibles de lectura fácil son términos además que aparecen en el propio proyecto de ley de transparencia que no

y son por lo tanto los términos que utilizaba el propio gobierno

también claro y que las modificaciones se publiquen pues sí

al gobierno para que lo tenga muy presente con esta moción y este acuerdo que se aprueba hoy

hoy en esta cámara por todos los portavoces de lo cual yo me alegro

recordar que en el principio de jerarquía normativa en la cúspide está la constitución y por lo tanto está muy bien recordar que

pero es que en este caso como en otros algunas veces entre lo que está recogido

una distancia que yo entiendo que todas las personas aquí presentes algunas no sé si con la misma motivación queremos que se vayan

una reforma de la ley de garantía de ingresos que se aborde desde el principio

aquí presente entonces obviedades sí obviedades seguramente pero algunas obviedades que no son tan obvias y que en el día a día

bastantes discrepancias discrepancias que además algunas veces toca gestionar a profesionales de lanbide que

y en otras ocasiones en muchas ocasiones que se traducen en suspensiones y en condiciones de vida desde luego poco deseables para las personas

de interpretaciones entonces yo puedo entender que efectivamente seguramente nosotras no hemos estado acertadas a la hora de buscar la forma jurídica o cómo eso se recoge o cómo se recoge en una jerarquía jurídica lo tengo claro

pero lo que sí conocemos es bastante de cerca cuál es la realidad

entre lo que se dice que se hace y lo que se hace porque la señora arregi komentatzen zigun irizpideak publikoak direla egia da eta

constantemente se funciona como

estuvieran en las personas perceptoras de la rgi cuando hay errores

pero otros errores corresponden a los problemas de gestión del propio lanbide

bienvenido sea este acuerdo aunque cuente con redundancias porque nos va a permitir avanzar nos permite avanzar además en un previo de un momento importante y

yo me felicito del acuerdo logrado creo que se avanza en materia de derechos sin autocomplacencias porque el punto de partida es de falta de transparencia

desde el escaño está claro que

pueden convertirse en una norma se ha cumplido

pidiendo por parte de este parlamento desde la anterior legislatura están publicados unos nuevos criterios

de este año y se recoge dentro de la enmienda transaccional el compromiso de que bueno evidentemente estamos ante una posible

de la renta de garantía de ingresos pueden variar cosas si en un futuro pudieran variar también los criterios de interpretación o de aplicación de todo aquello que pudiera ser modificado pues también se recoge

que seguirán publicándose en la página web los criterios que pudieran modificarse en un futuro

ahonda en el ámbito de la realización de la lectura fácil y mejora en las motivaciones de las resoluciones con el fin de facilitar a los

cualquier reclamación que tuvieran que realizar ante el servicio vasco de empleo yo creo que eso es positivo y la enmienda transaccional que

distintos grupos para llegar a un consenso para avanzar para recoger cosas

por mi grupo los socialistas vascos por el grupo eh bildu y el grupo

elkarrekin podemos y votarán a favor del mismo como ha manifestado su representante la señora garrido el grupo popular yo creo que eso es lo positivo para

me quedo también con lo que decía la señora kortajarena de que ello nos permite avanzar

alcanzado por unanimidad que lo que viene a pedir es que

ya estando cumplida la publicación de los criterios que es verdad que no se había hecho con anterioridad pero ya desde abril está hecho y en política isiltasuna mesedez los tiempos

que esto ya se está haciendo así

la previsión por si acaso de que en el caso de que se modifiquen pues que sean publicados y que evidentemente

desde que se publican lo cual compartimos y así se viene haciendo

es así porque además lo que hace es beneficiar al propio sistema y beneficiar

a la ciudadanía a los solicitantes de estas ayudas que verán y podrán basar sus denegaciones o sus supuestas

los criterios publicados para poder basar sus recursos solicitudes de revisión etcétera

parece que no es cierto es que usted decía señora guanche decía que el gobierno como instrumento los criterios y que se dejen de inventar la normativa y no la cumplan creo que esas acusaciones son graves y creo que en el caso que no se esté cumpliendo la normativa existen los procedimientos al respecto pero creo que unas acusaciones de ese pelo

a través de esta iniciativa volvemos a tratar en este parlamento un tema sensible y de enorme gravedad para nuestra sociedad como es la violencia hacía niñas niños y adolescentes y en especial la violencia sexual desde elkarrekin podemos entendimos que se trata de una iniciativa que pretende

se aborde desde un enfoque que en términos generales compartimos un enfoque que no se conforma con reaccionar desde la alarma la perplejidad o incredulidad que no se reduce a responder de forma puntual ante hechos irreversibles que se presentan como episodios aislados entendimos que esta iniciativa y entendemos pretende ir más allá proponiendo algunas medidas para su prevención para la alerta temprana la sensibilización y mejora de las acciones de atención y reparación un enfoque que promueve una postura responsable y comprometida con un fenómeno que está presente en toda las sociedades y culturas en la nuestra también

decidimos presentar una enmienda de adicción a la iniciativa presentada por eh bildu que sume y complemente este enfoque queremos que desde este parlamento se impulse una política integral tanto en las medidas que se lleven adelante como en la visión del problema

infantil es una de las múltiples formas de violencia que se ejerce hacia la infancia y la adolescencia el abuso sexual al igual que la explotación sexual la pornografía infantil la trata con fines de explotación sexual el turismo sexual

psíquica y emocional contra su libertad sexual contra el bienestar y desarrollo de niñas niños y adolescentes los abusadores

muy claro ya lo decía la señora etxebarrieta no son enfermos no son elementos aislados con patologías únicas son

padres abuelos tíos el cura de la parroquia de nuestro barrio el entrenador de baloncesto el señor que nos cruzamos todas las mañanas en la panadería en el autobús o el metro personas de absoluta confianza tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto son la expresión

que promueve valores que justifican y naturalizan el abuso de poder que promueven valores que justifican y naturalizan que se cosifiquen y mercantilicen

afortunadamente en las últimas décadas y gracias en gran medida a la histórica lucha de las mujeres y de las feministas

nos han quitado la venda de los ojos la familia que hoy en día todavía se nos sigue presentando como modélica

con hijos e hijas que se sigue utilizando machaconamente en publicidad prensa en iconografía o documentación de la administración pública

y os saldrá esta fotografía y sino también puede ver el cuadernillo de la prueba diagnóstica que se ha realizado desde educación por parte del gobierno vasco

llevaron a su casa a rellenar como decía hemos descubierto que estos espacios no siempre son el lugar de protección y cuidado que niños y niñas necesitan para su pleno desarrollo

muy al contrario nos demuestran que las niñas y niños están muy expuestos a sufrir violencia ejercida por adultos de su entorno más cercano y de máxima confianza más por ellos que por parte de desconocidos o

que a partir de diversos estudios internacionales se puede afirmar que una cuarta parte de todos los adultos han sufrido hemos sufrido maltratos físicos en la infancia una de cada cinco mujeres uno de cada trece hombres han declarado haber sufrido abusos sexuales

en el que el abusador actúa con impunidad estamos descubriendo una realidad que en muchos casos quedaba oculta cuando no favorecía su reproducción por el

el mirar para otro lado el no querer saber del mundo adulto y hablo en masculino no porque represente a dos géneros

es un hombre el que ejerce abuso sexual es hora de sacar la cabeza de debajo del ala durante la comparecencia en la comisión de derechos humanos e igualdad de eraikiz kolektiboa

visibilizando violencias que ha comentado la señora etxebarrieta afirmaron que se trata de la violencia más oculta en nuestras sociedades

no tenemos datos actualizados y sistemáticos se estiman cifras alarmantes se puede afirmar sin error la existencia entre un quince y un veinte por ciento de prevalencia

una de cada cinco mujeres de europa habrían sufrido abuso sexual en la infancia

mientras están sucediendo y el resto se conocen cuando las víctimas ya son adultas considerando que todavía hoy es un tema tabú rodeado de hermetismo estigmatizante

estos datos podrían ser solo la punta del iceberg de este grave problema social es hora de que este parlamento y el gobierno le otorguen la prioridad que le corresponde que esto también pasa aquí en euskadi en nuestra sociedad y afrontarlo con responsabilidad y con todas las medidas que sean necesarias es una vulneración de los derechos humanos

central en las preocupaciones y políticas que se llevan a cabo para avanzar para dar un salto cuantitativo y cualitativo en las políticas para la prevención detección precoz

atención y reparación en ese sentido desde elkarrekin podemos venimos trabajando en el impulso de diferentes iniciativas no queremos acciones o medidas elaboradas desde la alarma social

solicitudes de comparecencia a través de las cuales pretendemos disponer del mayor número de elementos posibles para una mejor comprensión

el veinticuatro de marzo tras la comparecencia a petición de nuestro grupo

presentamos una proposición no de ley que esperamos encuentre el acuerdo unánime de esta cámara

especializadas en la temática todas las personas que participaron en el proceso de elaboración del informe coincidieron en afirmar que la visibilización del abuso sexual infantil

en euskadi por ejemplo el último estudio de prevalencia realizado sobre el tema data de mil novecientos noventa y cinco déjenme que lo diga pero me parece una auténtica vergüenza en este estudio

afirman afirmaban haber sufrido abuso sexual han pasado veintidós años es evidente que nos faltan datos

combatir aquello que no conocemos nos dificulta promover medidas adecuadas a la realidad para erradicarlo es por ello que decidimos impulsar desde el parlamento la elaboración de un estudio sobre la prevalencia de violencia sexual hacia la infancia y adolescencia en los ámbitos de hogar y familia sistema educativo

comunidad sistemas de protección y de responsabilidad penal adolescente que contemple un diagnóstico actualizado y necesario para la elaboración de una estrategia integral un estudio que cuente con la participación activa de experta sociedad civil

en esta proposición no de ley a los siete puntos planteados en la iniciativa primera por parte del grupo

elkarrekin podemos aporta propuestas que tienen que ver con asegurar el ejercicio del derecho al acceso a la justicia con tener presentes las necesidades de niñas niños y adolescentes

con impulsar medidas desde todos los organismos en el marco de sus competencias para abordar de forma específica las violencias para la prevención

la atención protección y reparación y también

con más y mejores datos para la realidad de la infancia y la adolescencia nos alegra que esta cámara en su totalidad esté de acuerdo

y que hayamos llegado a un acuerdo unánime para que estos hechos que vulneran los derechos de niños y niñas adolescentes no se repitan esto solo es el principio quedan muchísimas

demasiadas animo al gobierno a seguir trabajando en este sentido y a ser rápido y contundente en la aplicación de todas estas iniciativas que se van a aprobar aquí

señores consejeros señorías probablemente este sea uno de los temas en los que todos podamos convenir que haría falta no tener entrañas

probablemente vulgar pero descriptiva y gráfica para no sentirse brutalmente conmocionado este es uno de esos fenómenos dramáticos

afronte la vida con un mínimo de dignidad le tiene que provocar una convulsión emocional ética moral de cualquier orden y esto es algo que afortunadamente nos une a toda la cámara yo tengo que agradecerle y darle la enhorabuena a la señora etxebarrieta por haber

en los que ha derivado el acuerdo porque es verdad que

políticas quizás no fueron las más acertadas pero

la posibilidad de juzgar injustamente al lehendakari no por ser el lehendakari sino cualquier persona

lo más acertado y creo que la proposición no de ley a la que hemos llegado es un acuerdo es más

y nos une a todos en la búsqueda independientemente de la tesis que tengamos ideológica sobre la que podríamos discutir mucho

nos une a todos en lo fundamental es el intentar encontrar fórmulas

dotarnos de las herramientas necesarias y adecuadas

la invisibilidad tiene otras derivadas y es que no se conoce el problema con lo cual no se conciencia nadie y con lo cual es difícil que se denuncie

la persona que ha sido objeto de abusos sexuales en este caso concreto adquiere la madurez suficiente y la valentía o se desprende de los miedos

y es capaz de visibilizarlo y de denunciarlo pero ya es probablemente la edad adulta el extraordinario problema o lo más dramático de este fenómeno

los menores son niños es gente que no cuenta ni con las herramientas intelectuales ni con las de ningún orden para ser capaz de sobrellevar un fenómeno que le trastoca profundamente y probablemente lo haga a lo largo de su vida denunciar probablemente a su padre o a su tío

estadísticamente más cometen este tipo de atrocidades y la pregunta que cabe hacerse es cómo somos capaces porque vamos a implementar medidas y vamos a intentarlo y seguro que con mucho acierto

para permitir que este fenómeno sea más conocido y por lo tanto haya una reacción más contundente pero la gran amargura es ser incapaces

porque la prevención es probablemente imposible porque el ámbito privado el ámbito familiar es particular evidentemente porque gente que parece magnífica luego no lo es gente que

más indefensa como es un niño cometer sobre él semejante atrocidad y compartiendo la proposición no de ley o la enmienda a la que hemos sido capaces de acordar y estando convencidos de que no es una firma meramente protocolaria por parte de ninguno de nuestros grupos y que a partir de hoy

que esto pasara a formar parte de la prioridad de nuestra agenda sí compartir con ustedes esa reflexión sobre la que tenemos oportunidad de trabajar seguro como somos capaces

dando importancia a la visibilidad dando importancia a la necesidad de que este fenómeno sea conocido y sea denunciado por quienes los sufrieron cómo somos capaces qué hacemos para intentar

que se le ha hecho a la proponente y también a todas aquellas que hemos formado parte

atendiendo al informe de eraikiz que es el que ha informado

que ha informado parte de la enmienda transaccional creo que

si de verdad lo situamos en el centro de la política podremos ponerle algún tipo de atención no digo que toda la resolución pero si algún tipo de atención pero empezaré por el principio que no ha mencionado el que dio origen

decía un hombre de cuarenta y dos años en febrero del dos mil diecisiete me robaron mi infancia mi ilusión y mi inocencia él

se acostaban con terror a la espera de la visita nocturna de su profesor que elegía a discreción

ellos tenían catorce años era el ochenta y ocho ochenta y nueve lo comentaron en el seminario lo denunciaron pero solo

y más silencio treinta años después se atrevió a escribir lo contó a la prensa y al abusador parecido al caso del ex vicario guipuzcoano se le condenó en mayo del dos mil diecisiete treinta años después a apartarle de la parroquia durante un año condenándole también a labores asistenciales a sacerdotes ancianos

y a otras tareas caritativas

a diversas penas expiatorias así como a sanciones administrativas y disciplinares a recluirse en un monasterio y a prohibir ejercer

caso en el otro caso en todos los casos en los miles de casos de abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia romana de la iglesia católica que un sacerdote abuse de un niño es un escándalo mayúsculo pero que después se produzca la connivencia de los superiores de los conocedores

pueda salirse de rositas con diversas vías expiatorias medidas administrativas reclusión en un monasterio reflexión y meditación extiende la magnitud y las responsabilidades de estos escándalos a las capas superiores de la iglesia católica por eso diré alto y claro que estos asuntos no son lo primero asuntos

que constituyen además un delito en todo el maltrato infantil pero es que además de

no es un asunto privado ni un asunto de la iglesia católica sino que es un asunto público que nos incumbe

responsabiliza nos interpela a todos los poderes públicos

han dicho mis compañeras y borja cuando ha intervenido anteriormente

más graves del maltrato a los niños es de extraordinaria gravedad tiene consecuencias en su vida en su entorno y en todos y cada uno de los contextos en los que el niño o niña víctimas se desarrollan de ahí que los ámbitos para la intervención lo han dicho todos

al legislativo y a nosotros la política y la política pública eso es lo que hemos consensuado aquí todos y todas asesorados por los que han tenido a bien realizar un informe sobre por otra parte tan oculto y tan silenciada porque sigue siendo lo han dicho invisible silencioso complejo oculto de difícil tratamiento donde la información escasea y las tasas de incidencia son muy superiores habéis hablado de números a lo que se cree es una violencia que es en el ámbito privado en ese sentido no es pública

acostumbra a dejar evidencias físicas lo que complica la detección externa es una violencia

porque es una violencia silente que pasa desapercibida y que cuando

en el entorno y en la propia víctima y han dicho mis compañeras también porque eso ocurre así además es una violencia que no lleva normalmente aparejada la agresividad no lo comentaba también en su narración

del exvicario de gipuzkoa que decía no hubo violencia física no me forzó pero se aprovechó de que era un niño que estaba solo que tenía confianza en él

y eso es también una violencia muy cercana dice el informe eraikiz el enemigo como llegan a explicitarlo

cuanto más pacifica es una sociedad en su conjunto

la violencia ejercida por los extraños y aumenta desgraciadamente la violencia de cercanía la que es más difícil de identificar y más complicada y de visibilizar en esta violencia también me repetiré no hay perfiles ni en los abusadores ni en las víctimas ni en las abusadas tampoco está relacionadas con las patologías o enfermedades

y asimismo no tiene nada que ver con otros factores pero sí está influida por los que han mencionado algunas de mis compañeras intervinientes la inexcusable incidencia de la dependencia de la infancia las relaciones de poder el patriarcado y la paradoja de la sexualidad infantil que ha pasado de la negación

igual que también hay factores que tienen que ver con las situaciones de amparo y vulnerabilidad mayor ahí hablamos de la desestructuración familiar la violencia intrafamiliar la exclusión social y la diversidad funcional

su permiso sin querer aburrirles hablando de la iglesia y el perdón pues tenemos pecado

hemos tratado a nuestros niños y a nuestras niñas y los expertos nos han dado de bruces con la realidad ahora la infancia es verdad que tiene protección más que la que nunca tuvo pero supeditada

por no creer a los niños y niñas cuando denuncian los abusos y por someterlos a largos periodos dentro del entramado judicial para dilucidar la veracidad de estos abusos y claro es que la infancia no oye no escucha no opina no se entera y claro se escucha por ella se opina por ella se decide por ella como un mero tránsito a la edad adulta

su valor y se denuncia porque si algo dijeron claro también las informantes en aquella comisión es que los niños y niñas no mienten los niños y niñas no tienen capacidad

ni de mantener una mentira cuando es por mucho tiempo por un tiempo determinado

a todos y a todas de hacerla visible no me voy a reiterar en lo que hemos acordado porque lo comparto todo pero la dimensión pública

que afecta a una persona a la que se produce una agresión un dolor

a su identidad y a su proceso de recuperación

visibilización y dimensión pública solo voy a llamar y pedir ayuda no solo a los que tenemos la obligación sino también a los medios de comunicación muchas veces esto se ha sabido gracias a ellos porque penalmente había prescrito y haré una especial llamada de atención a los juzgados

si bien están las leyes las leyes no están protegiendo a nuestros niños y niñas insisto no mienten antes al primero al que

le comentaron cuando lo denunció en los campamentos

es tu palabra contra la del señor exvicario

javier gardoqui josefina solozabal aurelio legarreta

elierobarrutia maria santa bilbao uriona behi

también qué difícil es saber qué sintieron hoy hace

los franco los mola y los sanjurjo quizás en estos momentos se saludaban no sé como si es así con la izquierda la derecha bueno justo esta semana hemos visto unas imágenes en las que estaba

o con la derecha se saludaban y quizás se felicitaban

de la operación por la lección que habían dado en gernika que además

lleno de simbolismo para euskal herria y hoy hace ochenta años también los aparatos de propaganda del fascismo preparaban su relato

un relato que a día de hoy sigue manteniéndose oficialmente ayer precisamente

en la comida coincidí al lado mío se sentó un periodista alemán era muy joven

en el acto previo cuando el representante del gobierno colombiano citó a mariano rajoy como valedor del proceso de paz pues hubo murmullos en la sala yo también

y le dije pues bueno que no sabía quizás que podía ser porque

mariano rajoy puede tener cierta relación precisamente con quienes bombardearon la villa

mesedez isiltasuna y le dije también por ejemplo

los descendientes de la legión cóndor pidieron perdón

hitz egiteko jarraitu mesedez pues le dije
que los descendientes de la legión cóndor como él pudo comprobar minutos antes habían pedido perdón

habían pedido perdón en nombre de sus familias y que aquí por ejemplo todavía nadie ha pedido perdón oficialmente

del ex ministro de justicia en aquel funeral y me preguntó sorprendido también no está prohibido

verdad justicia y reparación egia justizia

gracias señora presidenta el tema es importante el tema es grave

hay gentuza que utiliza la memoria

para manosearla para manipularla para ensuciarla

de la confrontación y no símbolo de la convivencia

del acercamiento del hermanamiento yo también he estado en gernika estos días señora agirre yo también he estado yo también he oído al alcalde de rostock

y a los descendientes de la legión condor y yo también he visto

y los testimonios de la persona que hicieron una representación extraordinaria el pasado día

gogora la verdad es que un acto emocionante y yo me emocioné como lo he hecho en otras ocasiones

muchas veces pero no utilice la memoria

no la ensucie no la manipule no la manosee no insulte

y si yo le digo que usted es colega o que es descendiente

o a fernando buesa o a más de ochocientos víctimas

sería lógico que lo hiciera en un debate como ese sería lógico que lo hiciese en un debate como ese

actos como el de gernika el otro día otros años anteriores nos han concitado allá hemos sentido

hemos sentido la amargura el horror la solidaridad ochenta años antes hemos sido testigos ahora recordamos lo que pasó y con eso nos quedamos y nos sirve a todos y vuelvo a decir gernika se planteaba como un elemento de convivencia eso sí que son nuevos tiempos ese recuerdo esos símbolos que han provocado a través del cuadro de guernica pero a través también de lo que significa gernika

de la guerra de la sublevación de la injusticia del bombardeo indiscriminado de los alemanes o de los italianos o de los franquistas o de los que fuesen sobre ciudades

pero usted no tiene derecho señora presidenta la señora agirre no tiene derecho

de lo que ya ha hablado muchas veces y muy claro en relación con las cuestiones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y con la defensa del respeto institucional algo que

mire vuelvo al tema porque el tema también es relevante pero no es nuevo el tema no es nuevo hemos hablado muchas veces en el parlamento de esta cuestión

en mil novecientos ochenta y uno en mil novecientos ochenta en el mil novecientos noventa y dos

en esta misma iniciativa hemos hablado de esa posibilidad de ese asunto lo hemos hecho históricamente en este parlamento nosotros nunca nos hemos opuesto a que el

en condiciones óptimas y previos informes

después de haber destruido una posibilidad de hablar

de porque no va a venir a euskadi si los expertos piensan que es bueno de hacer una exposición temporal en el guggenheim en el artium en gernika donde haga falta pero es que no merece la pena contestarle señora

usted no entiende guernica eskerrik asko barrio jauna

gracias señora presidenta

por partes porque yo creo que de todo lo que se ha comentado

y la propia justificación de la propuesta de resolución hacía referencia a la memoria y es a lo que hablaré en un segundo punto porque quiero explicar en primer lugar el contenido de nuestra enmienda no voy a repetirlo porque

reiterativos en todos ellos ha habido alguna circunstancia nueva pero el grupo socialista manifiesta como en todas las ocasiones anteriores

traslado que se solicitase de este obra pictórica pero que cualquier acuerdo sobre ese traslado

deberá ser consecuencia de criterios técnicos que lo avalen criterios e informes técnicos que garanticen su integridad y su conservación para nosotras para nosotros es lo principal lo primordial y lo fundamental por encima de todo está la integridad y la conservación de una obra referente de la pintura contemporánea

ni político ni partidista ni económico ni museístico que lo que se refiere a nuestra propuesta y se contiene en nuestra enmienda de totalidad

ni lo ha habido antes ni lo hay ahora nos comprometemos con ese interés

la proposición no de ley que hoy nos ocupa en modo tiene a nuestro entender

de conservar esa obra integra y en las debidas condiciones es más hay ocasiones en las que nos parece ni lo ocupan ni le preocupa se limita subrayar

cuáles son esas instituciones cuántas y cuáles son las instituciones que van a intervenir

dónde está el informe quién va a hacer el informe para ese traslado qué órgano o institución se va a responsabilizar de la viabilidad técnica de este traslado quién realizará el informe quién o cuál institución se va a responsabilizar de los daños que pudiera sufrir la obra en ese traslado si es que hay algún problema y se produce ese daño irreparable

del traslado de esa obra en caso de que se pudiera realizar nos parece

en ese sentido una propuesta para una petición de estas características si se quería de verdad y no se quería otra cosa escasamente fundamentada

universal imprescindible insustituible

serían de imposible compensación de imposible compensación las condiciones deben

ni siquiera ya es de picasso o de los legítimos propietarios que es el gobierno de españa siendo primero el gobierno de la republica que lo encargó tampoco de nosotros no es nuestro no es propiedad de nadie porque es patrimonio de todas las personas por eso no compartimos su atrevimiento al justificar la iniciativa

de sentido más allá de la ciudad de gernika con todo mi cariño y ese evidente respeto

y eso lo compartimos todos y todas en esta cámara y más allá de esta cámara tiene un sentido y una sensibilidad

de euskal herria de españa y de europa tiene nombre y tiene espíritu propio tiene un símbolo autónomo que grita contra el horror de las guerras y de la violencia

y eso es algo que se comparte políticamente

nos parece una propuesta decirlo de esa manera insisto desde el debido respeto escasamente fundamentada porque más allá de entrar a valorar si el guernica de picasso debe ser o no trasladado

está claro que los acuerdos deben de conservarla cuando menos

que garantice que va a estar íntegra y bien conservada cuando se traslade y esto es lo mismo que dice anny

en febrero del dos mil diecisiete y ahí no hay voluntad política o alguien puede mantener que

una profesional de estas características tiene una voluntad política espuria en privar a

a euskal herria a bilbao a san sebastián a madrid a barcelona

creemos que lo que nos ocupan aquí son preocupaciones incompatibles porque para el grupo socialista no hay razón política alguna tampoco la suya permítame

esta obra no tiene fronteras y no queremos ponérsela nosotros

y se ha dicho por activa y por pasiva entonces no acabamos de entender que se haga de depender su trascendencia histórica y artística a dónde esté ubicada

y de nosotros es una visión excluyente porque ese nosotros excluye a otros

pasados y recientes miles de muertos excluidos algunos ha leído usted de los que fueron víctimas en aquel

a los que se produjeron consecuencia de otros bombardeos fascistas de otros bombardeos franquistas y de otras agresiones franquistas y fascistas que se produjeron en otros lugares fuera de gernika y de euskal herria que también

el guernica es presente y el guernica nos incluye

el guernica también es alepo antes me comentaba usted antes

venía la legión condor la amama de edu madina comentó el otro día en la ser que

y vio pasar cuando iban a tirar las bombas

que se sentía muy pequeña fíjate edu madina al que también sufrió un bombardeo mucho tiempo después

porque es frente a la intolerancia y frente a la violencia venga

es de todos y de todas es de todos y de todas entonces no me caben las exclusiones porque no cabe un nosotros ni un nuestro no se entiende solo el guernica

yo puedo entender para ustedes y para muchos de los presentes de las presentes que puedan usar ideal natural pero no tiene por qué ser porque lo digan ustedes porque gernika

también se entienden la una sin el otro la ciudad de gernika tiene nombre propio en el relato histórico

su propia historia nunca fue un símbolo que representase solo la tragedia y

alzamiento franquista picasso pintó esta obra encargada por el gobierno de la república para ensalzar las libertades y demonizar las guerras y no debería

con el límite del relato histórico de los profesionales pero no hagamos lo que debe ser una memoria compartida e inclusiva

porque lo mismo que afirmamos los y las socialistas con respecto a nuestro pasado reciente

no confundan lo común con lo propio ni lo suyo con lo nuestro porque lo que no vamos a hacer en este asunto de memoria histórica es olvidar a tantos

republicanos socialistas anarquistas comunistas nacionalistas que defendieron

en euskadi y en españa y otros muchos y muchas desde fuera de españa

fue una tragedia que lamentamos y que recordamos

también las interpretaciones no son únicas son compartidas no hagamos de lo que es de todos algo

o que nos haga polvo muchas gracias eskerrik asko romero andrea

aseguran la posibilidad de transportar obras de arte sin riesgo ninguno siempre que se destinen los recursos adecuados personal cualificado

exista planificación y diligencia necesidades a las que de las instituciones vascas no nos hemos negado

ya con motivo del setenta aniversario del bombardeo de gernika

se comprometió a buscar los medios necesarios para

hay que decir que no estamos claramente ante retos técnicamente insalvables para la conservación

en un traslado y sí como he mencionado a una decisión política que debe de ser analizada y negociable picassoren obra

si tenemos en cuenta que los informes técnicos a los que hacemos mención

se puede entender que las grandes innovaciones en tecnología también se podrán aplicar para la salvaguarda de esta obra y el porqué de pedir el traslado a gernika

cuando fue bombardeado no lo fue por ser objetivo militar dentro de la guerra experimento una práctica de guerra sobre la población civil zoritxarrez

bonbardeoak errepikatu zituzten por eso digo que el guernica de picasso es un símbolo

y el grupo nacionalistas vascos creemos necesario seguir

a la que se hace referencia en nuestra enmienda de adición al texto presentado hoy en esta cámara por eh bildu

como hoy lo estamos haciendo con motivo de este ochenta aniversario eta

creado para contar la verdad y no sé si hoy ha sido utilizado y me decepciona la verdad lo digo con absoluta sinceridad

parte de la verdad a nuestro grupo no le parecería mal y no le parece mal a priori la vieja reivindicación de que el guernica se ubique y sea expuesto

de hecho diré que la primera persona que lo propuso en este parlamento aunque luego tuvo un recorrido político diferente era el entonces parlamentario y secretario general del partido comunista de euskadi en mil novecientos ochenta

uno de ellos ya se ha mencionado desde luego que es el que tiene que ver con la conservación

y otro es el que tiene que ver con el contenido sí político que lo tiene

y contenido político histórico del que no podemos hacer desprender

a esta obra yo por eso voy hacer en nombre de mi grupo de nuestra coalición

esta iniciativa una primera técnica

una segunda consideración político histórica y una tercera consideración que tiene que ver con los deseos del autor que son unos deseos importantes y que tienen que ver también con el contenido político histórico

técnicamente ya se ha dicho también por algún grupo el traslado hoy en día es difícil sino temerario lo dicen los técnicos del reina sofía pero lo dice la mayoría de expertos que se han pronunciado

como mínimo la opinión de todos estos expertos nos merece la duda razonable hay que tener en cuenta

tuvo más de cuarenta y cinco complicados movimientos teniendo en cuenta también las dimensiones

o sao pablo para acabar finalmente en el moma

desde el casón del buen retiro en el año mil novecientos noventa y dos los expertos decían

podrían generar serios problemas a un cuadro que no está en buenas condiciones no obstante desde luego desde nuestro grupo no nos cerramos a que si hubiera informes que permitiesen o se considerasen favorables a poder moverlo a reconsiderar

la posición pero hay una segunda consideración que tenemos que hacer que tiene que ver con el contenido político histórico

y voy a intentar explicarme compartimos con el grupo promotor con eh bildu

es conocida en el mundo entero porque denuncia de viva voz la guerra y la represión de los derechos humanos pero esta obra para nosotros es mucho más que la denuncia de la guerra y la represión de los derechos humanos no se trata solo de la denuncia de la guerra en abstracto

sin la población que le dio nombre y en esto también estamos de acuerdo tampoco puede ser entendido sin el contexto histórico en el que es creado puesto que la propia obra es producto directo de ese contexto

como ya se ha dicho también fue un encargo del gobierno de la república del gobierno del estado legítimo en aquel momento

el gran muralista del partido comunista que en aquel momento ocupaba el cargo de director de bellas artes de aquel gobierno como decía legítimo

por el golpe y por las potencias bélicas de la alemania nazi y la italia fascista la iniciativa

en la exposición internacional de mil novecientos treinta y siete en parís como denuncia

quienes con la ayuda de potencias extranjeras habían comenzado una agresión al gobierno democrático

en todo el conjunto del estado pablo picasso y perdonen que lo diga también militante de mi partido se identificaba en el gobierno de la

y realizó por eso esta obra de gran aportación a aquel gobierno asediado

exposición de parís como denuncia de la barbaridad que se estaba cometiendo contra la democracia

fue una acción terrible que los fascistas lanzaron contra la población civil para doblegar a la república y a las fuerzas democráticas bombardeos que se realizaron en diferentes ciudades en euskadi y en el conjunto del estado y que en el caso de gernika tuvieron resultados especialmente devastadores

comprometido con su tiempo y con aquel gobierno agredido

como estandarte de la denuncia de lo que estaba sucediendo en españa un bombardeo que efectivamente fue negado por sus autores en aquella propaganda que se hizo en los años treinta

fue por lo tanto concebida como una denuncia de aquella agresión bélica que estaba sufriendo el pueblo en aquella guerra

por la propaganda en europa por esta razón desde nuestro grupo

del conjunto de todos los pueblos de españa agredidos por aquel levantamiento fascista y golpista

es eso pero es mucho más que eso y de ahí también su valor universal entendemos el valor simbólico que el guernica de picasso tiene para todas las ciudadanas vascas

y también le reconocemos su valor universal como denuncia de las atrocidades de las guerras y las vulneraciones de los derechos humanos

de denunciar y dar a conocer al mundo lo que pasaba en aquella guerra lo cual sigue siendo necesario en un estado donde las víctimas de aquel levantamiento siguen enterradas en cunetas y en fosas comunes por toda la geografía

claro que sí desde luego que sí pero lo importante en nuestra opinión no es tanto el dónde sino el cómo puesto que lo fundamental es que la obra y su historia sea conocida

y sobre todo que siga cumpliendo aquella función que tenía en mil novecientos treinta y siete denunciar la bárbara agresión que se emprendió contra los pueblos para derribar un gobierno democrático violando para ello los derechos humanos más elementales como en el caso terrible

una tercera consideración si me da tiempo tiene que ver con la voluntad del autor de la obra ayer o antes de ayer podíamos leer en la prensa que la voluntad de picasso era que la obra volviese a españa cuando llegase la democracia y las libertades

pero no es completo puesto que la intención del autor era que el lienzo formara parte de la memoria visual de la guerra civil y que no la quería en cualquier españa es conocido el celo del autor con este tema es conocido el episodio

en mil novecientos sesenta y ocho de aquel episodio aquellas palabras de picasso

solamente volverá a españa con la república lamentablemente

pero tenemos que decir que la voluntad del autor aunque no sea lo más importante sí es importante por ese concepto

vinculado a aquel pabellón que tenía unos objetivos concretos y hay que decir que el reina sofía está haciendo también un excelente trabajo en ese sentido pueden ustedes ver cuando entran la escultura

esta cuestión estas son las consideraciones generales por las que nuestro grupo considera que no podemos apoyar esta iniciativa partiendo de la afirmación que hice al principio de que no nos oponemos a que el guernica pudiera estar en gernika pero no se dan las condiciones para que esto pueda ser así y lo décimos con todo el corazón

entre españa y euskadi lo más alejado porque para nosotros sí que el cuadro tiene un contenido político importante la denuncia de la guerra y como decía no en sentido abstracto por eso creemos que debemos ser cuidadosos para garantizar la mejor conservación de la obra tanto la conservación física como la conservación

o conservación intelectual de la obra dos cosas sin embargo

una es el estado al que ya me he referido podía estar en nueva república como quería

y también esa gran pinacoteca en la que se sitúa en vez de llevar el nombre de una señora griega que no ha hecho nada por la cultura
podía llevar el nombre por ejemplo de museo público de arte contemporáneo pablo picasso o josep renau eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

y entiendo muchos más pueblos yo vivo en durango entiendo durango

señora romero y entiendo kobane y entiendo muchos pueblos que todavía hoy están sufriendo la guerra

en un artículo en el país de john carlin que era muy español el tema este de la indignación lo que he palpado hoy aquí

pose de superioridad moral esa pose que sufrimos aquí muchos

no pretendo de ninguna manera sentirme ni mostrarme moralmente superior a nadie

y le voy a decir por ejemplo le voy a recordar que en melilla hace unos días los honores

el presidente de melilla el tal señor imbroda que es precisamente senador del partido popular

que dijo que el franquismo ha asentado las bases para una españa en orden un señor fraga iribarne que no llegó a condenar nunca el franquismo

en cuanto la señora romero y a podemos

especialista aquí en conservación y restauración de obra pictóricas sí que os doy la razón que el cuadro está muy dañado

traslados que ha sufrido pues bueno sí que es una cuestión seria pero nosotros lo que estamos pidiendo aquí es el último viaje el último traslado y si hemos conseguido llegar a luna pues supongo que

de madrid a bilbao si es que en realidad hay voluntad para ello en cualquier caso en la labor de este parlamento no creo que sea hablar

en cuanto a podemos estoy de acuerdo que tiene una valor universal

que lo universal también tiene que ser singular y fue precisamente su autor quién eligió

como parte por el todo y hasta donde yo sé gernika también es parte del universo lo que queremos

todavía mucho mejor y bueno pero lo que decía nuestra labor aquí no es

mostrar voluntades políticas y esa es nuestra obligación aquí y precisamente el cuadro

se creó desde una motivación política ya lo han repetido aquí distintas personas se creó por encargo de la república de la

por motivos políticos también estuvo en estados unidos o no lo trasladaron a españa hasta que murió

y por motivos políticos también pedimos hoy aquí

yo creo que su discurso se ha transformado en irrelevante parlamentariamente yo creo que

de esto nada de lo qué es el parlamentarismo provocar manosear una memoria que es de todos

también con las expresiones sigue tratando de utilizar un recuerdo limpio

utilicen esa estrategia sí que me quisiera referir en cualquier caso a lo que ha planteado la señora betolaza y nosotros sí que nos hemos referido a las cuestiones técnicas hemos hecho una enmienda de totalidad en debates anteriores de hace varios años no solamente del dos mil diez sino de años anteriores

y además en relación con que si se despejan esas dudas y esas imposibilidades pues que venga a euskadi que venga a una exposición temporal pues

y que se utilizan en momentos determinados en simbologías determinadas en momentos históricos para ser expuestas en ese sentido ojala ojala

asistiendo ahora hay un el museo reina sofía tiene una muestra se llama piedad y terror de picasso el camino a guernica

de la creación de la obra y según los expertos siguen diciendo que la obra está delicada por el paso de los años

requerirá trabajos de conservación que ya están siendo estudiados es tan delicado dicen los expertos dice el director

ni quitar del bastidor porque ha tenido viajes muchísimos años y está mal incluso se dice que este deterioro

algunas zonas de la pintura está sufriendo desprendimientos todavía está sufriendo desprendimientos es decir que el movimiento puede ser lo que

que ya se está estudiando algo que según matizan los expertos no constituye propiamente una restauración el guernica no se va a restaurar pero se está procediendo

estudio en el que ya está desde hace tiempo desde hace años es decir cuando ya hablábamos en dos mil diez

restaurar no restaurar limpiar conservar barnices no barnices poner pintura no poner pintura bueno es un debate

muy ligado a la restauración a lo artístico o a la conservación artística que bueno se nos escapa a todos nosotros pero lo que sabemos hoy es que no se puede mover el guernica hoy pero

si algún día se resuelven esos problemas técnicos esos problemas de conservación de reposición o no de la pintura lo que sea

y desde luego como hemos dicho en nuestra enmienda de totalidad

nosotros decíamos que instábamos al gobierno de españa

para que si los informes técnicos referidos a su estado de conservación no lo impiden permita y facilite

de picasso a alguno de los museos del país vasco que garantice las óptimas condiciones de custodia y exposición bueno no hemos hablado de gernika porque hay museos

en el país donde las condiciones son óptimas para una exposición de esas características al mejor nivel o al más alto nivel de conservación y de garantía y de protección

de carácter político en diferentes sentidos yo creo que bueno pues está bien está bien saludar está bien señora el

esencia política la definición política de un cuadro

tiene todo el derecho y toda la legitimidad del mundo a reclamar determinado parentesco determinada afinidad con las cuestiones ideológicas claro que sí esa es la historia de españa

estuviera en españa junto con las libertades por eso perfectamente podría estar en gernika perfectamente porque estaría en españa

puedo aseguraros que no lo soy por eso lo que hago es informarme de lo que opinan los que saben de arte

unos méritos tengo pocos pero sé que ese no se encuentra entre ellos sin saber

tampoco he utilizado creo una actitud

antes y ahora para nosotros es prioritario que en cualquier acuerdo de traslado al que como ha dicho también el portavoz de podemos

se acompañen de unos informes que puedan acreditar que se conserva

lo he dicho bien claro lo he dicho bien claro lo único que he dicho que usted no hace referencia a esos informes sin más indignación

para todos los vascos y también lo es el picasso

también el señor hernández como algo solo nuestro no es nuestro no es todo nuestro nosotros nuestro nosotros nuestro nosotros y menos

y con esta villa que ha conseguido representar los valores que ha conseguido representar el cuadro de picasso es una ventana abierta todo el mundo grita de dolor

en españa en ese momento no solo el pueblo de gernika porque no solo se hizo un experimento con gernika le puedo decir que en la serena hoy que ha salido aquí

muchos experimentos fascistas de persecución de las personas no solo enterrarlos

sino señalarlos hundirlos en la miseria se hizo y se les escondió sí también fue un símbolo y yo considero que ese grito ese grito comparte usted conmigo que también está en el guernica

porque lo que ocurrió aquella vez es que

efectivamente que fueron las víctimas pero permítame sin parecer ni indignada ni impostada que acabe la intervención porque

es que va a llegar pronto lo de la república a lo mejor tarda un poco más viendo como están las prioridades de los partidos a la hora

lo que supone la exaltación de las libertades que también supone además de la lucha contra el terror

porque yo me siento especialmente orgullosa de aquellos milicianos que fueron leales a la república

a quienes se sumaron los gudaris nacionalistas a quienes se sumaron otros civiles llegados de otros puntos de españa para defender nuestra tierra del fascismo

es artxanda y es bilbao es madrid cartagena

son tantos miles de ciudadanos que

huían todos huían todos de lo mismo huían todos de la guerra del franquismo y del

eskerrik asko de manera breve porque creo que antes ya he explicado nuestra posición y por qué razón no nos oponemos a que el guernica se exponga en gernika o a que incluso

pero por qué no podemos votar a favor de esta iniciativa

técnicas yo no me considero ni creo que en mi intervención me he considerado especialista en conservación

poco tiempo y que siempre me he referido a los expertos yo no sé valorar en qué condiciones está

pero la mayoría de los expertos dice que no está en condiciones pero también es verdad que he dicho en mi intervención que si hubiera nuevos informes

en base a esos informes podría reconsiderar nuestra posición porque nos parece que la conservación física del cuadro cuando menos tiene que ser tenida en cuenta y yo no hago valoración sobre si está en condiciones o no de venir nosotros lo que hemos dicho

el partido nacionalista vasco ha mostrado algún ejemplo de algún experto que dice que sí pues muy bien nosotros desde luego no nos oponemos ni nos opondremos nunca a que haya nuevas valoraciones

y en base a eso posibles cambios de opinión y comprendemos también perfectamente

que el universal es también local por eso también he dicho que no nos podemos oponer a priori a que el guernica esté en gernika porque efectivamente

y para lo que fue creado podía transmitirse perfectamente

como podría transmitirse en madrid como podría transmitirse en durango eso es verdad y por lo tanto nosotros también estaríamos de acuerdo en eso y también estamos de acuerdo en que gernika pues tiene también una vinculación especial con el cuadro claro

y esa es una de las razones que llevó a picasso a pintar el cuadro

en que sobre la guerra aquella guerra se estaba mintiendo y que aquel gobierno legítimo tenía una necesidad perentoria de explicar al mundo lo que aquí pasaba

surge también como he dicho antes la universalidad de la obra

cuando el partido popular el señor carmelo barrio dice que picasso quería que el guernica estuviera en españa no estamos de acuerdo quería que estuviera en españa sí pero hay un matiz no era en españa porque sí

dónde geográficamente sino el cómo

y aquella madrid capital de la república antifascista de la que él hablaba era ese el espacio y la explicación

generarle el entorno de aquella exposición universal de parís la explicación de todo lo que hay en el origen de ese cuadro está en el centro en el corazón de la obra de picasso no era tanto el dónde sino el cómo

lo que pasó en aquella guerra y más aquí en este lugar en este estado o llámenlo como quieran porque yo no pretendía venir aquí a hablar

pero lo que aquí pasó que fue una

agresión contra la democracia y contra los derechos humanos y que fue negada y que aquel gobierno que fue cercenado se vio en serias dificultades para poder explicarlo al mundo

en su compromiso realizó esta obra nosotros desde luego no pretendemos polemizar ya décimos

que madrid sería un buen lugar para exponer el guernica que barcelona sería un buen sitio para exponer el guernica

que málaga sería un buen sitio para poner el guernica pero no es tanto el dónde sino el cómo y el qué que se explique y muchas veces tenemos la sensación de que todo el mundo cuenta su parte de la historia y su parte de la verdad en lo que sí también nos comprometemos porque parece que se ha hablado un poco más de esto casi que de la obra es reiterarnos en nuestro compromiso contra ese tipo

fascistas que en aquel momento asolaron en el estado